hablar de nuevo de e i te be por motivos en principio ajenos al asunto que traemos hoy aquí

de mesura no vaya a ser que algunos estén más interesados en cargar contra nuestra radio televisión pública vasca al servicio

a lo público en general o también para azuzar guerras culturales e identitarias que no encuentran reflejo en las calles de euskadi lo dijimos y lo repetimos

y que hábilmente montado para su difusión en redes sociales pudiera parecer dirigido a ofender y a reírse de los españoles poca gracia para algunas que se han podido sentir ofendidas como el error se ha reconocido

ocupémonos por favor hoy de hablar de la reforma de e i te be que traemos aquí

de medios para el desarrollo de su carrera al servicio de la ciudadanía vasca sin intromisiones políticas de ningún tipo porque han sido las intromisiones políticas al servicio del partido lo que ha lastrado la posibilidad de tener un medio público de referencia

a los estándares europeos para lo cual se hace imprescindible actualizar la ley de e i te be

a su composición funciones y atribuciones que la ley les confiere entendemos que es imprescindible desgubernamentalizar los medios públicos

pluralismo y la calidad de sus contenidos en consonancia con estos objetivos el actual sistema de gobernanza que data de una ley

la elección de las personas que forman parte del consejo de administración debería realizarse en base a criterios de profesionalidad en un proceso transparente y público el actual sistema de cuotas se limita simplemente a duplicar en el equilibrio de fuerzas

en el parlamento pensamos que este no es un buen sistema para garantizar

mesedez sino para asegurar el control político que es del todo incompatible con una gestión basada en criterios profesionales

refundación nuevo modelo de gestión modernización etcétera nosotros proponemos con esta propuesta de ley una serie de medidas concretas y realistas

que todos los grupos dicen querer por ejemplo empezamos por la reforma del propio consejo de administración tal y como dice el consejo de administración estaría compuesto por once personas de las cuales seis serían elegidas en el parlamento respetando por supuesto la paridad de género de tal forma

las personas candidatas deberán comparecer en el parlamento para avalar su idoneidad las otras cinco personas miembros del consejo de administración serían elegidas de la siguiente manera

y dos por parte de las personas trabajadoras del ente público se respetaría igualmente en esta elección la paridad de género las personas candidatas a formar parte del consejo de administración deberán acreditar una trayectoria profesional reconocida en el sector de la comunicación y el audiovisual

la duración de su mandato a seis años para que puedan ejercerlo sin estar sometidos a los tiempos de la vida política con sus ciclos electorales y a los del parlamento por otra parte defendemos que al finalizar este periodo

de tiempo no superior al de tres meses el consejo de administración tiene además

que ha hecho que en la práctica haya sido complicado que aprobara anteproyectos de presupuestos proponemos modificar el artículo que corresponde a esta elección para agilizar este trámite

para su aprobación además apostamos por una profesionalización

se realizaría en base a las distintas propuestas de los grupos parlamentarios

las personas candidatas a formar parte del consejo de administración deberían de acreditar como decíamos antes una trayectoria profesional reconocida pensamos que la mejor manera de despolitizar e i te be que el consejo de administración sea un órgano compuesto por profesionales de la comunicación siguiendo el modelo de países como reino unido o noruega además

órgano el consejo social un órgano máximo de dirección y de control interno

en la fijación de los principios generales de gestión de la radio televisión pública y vigilar su cumplimiento este órgano compuesto por quince miembros y su composición sería por supuesto paritaria es evidente que el hecho de no contar con una ley propia de comunicación

cuyas funciones serian la vigilancia control y sanción de los medios de comunicación social

nuestra apuesta por la participación de la sociedad civil se concreta en la creación de este consejo social serían competencia del consejo social la fijación de las líneas maestras del contrato programa garantizar el cumplimiento del derecho de acceso y evaluar el cumplimiento de la función pública

tema también en boca de todos últimamente proponemos un sistema de elección por convocatoria pública y en base a proyecto el director general sería designado por el consejo de administración que elegiría mediante

en base a su currículum y al proyecto que presente bajo los principios de igualdad y capacidad no es de recibo que la dirección de e i te be haya recaído sistemáticamente en personas cuyo único mérito ha sido el de tener un determinado carnet

asistiera con voz pero sin voto a las reuniones del consejo de administración

proponemos que sean elegidas las personas que ocupen los cargos directivos

también que estén obligadas como la dirección general a una rendición periódica de cuentas en la comisión de control de este parlamento y también añadiríamos

preceptivo para la designación de la dirección general por último incluimos también la reprobación por mayoría cualificada del parlamento

no es de recibo tampoco que quien haya sido censurada por la mayoría de los representantes políticos del parlamento vasco siga ejerciendo sus funciones

estas son en lo fundamental las propuestas de la modificación de ley de creación de e i te be que elkarrekin podemos trae hoy

para su trámite recogiendo recomendaciones diagnósticos y orientaciones de expertos de medios públicos de comunicación personas trabajadoras sindicatos y otros agentes pensamos que son propuestas concretas realistas y viables

para aterrizar las ideas de participación transparencia independencia y rendición de cuentas somos conscientes de que deben ser sometidas a discusión y a debate

y de que a buen seguro nos hemos podido dejar aspectos relevantes sin tratar pero hoy cumpliendo con nuestra obligación

y las personas que trabajan en e i te be les traemos aquí para empezar ya de una vez por todas

lo hemos dicho y repetido la reforma de e i te be lleva un retraso que nos parece inaceptable ha llegado el momento de que todos los partidos muestren su compromiso real y pongan encima de la mesa propuestas concretas que puedan debatirse en esta misma legislatura adquiriendo el compromiso de reforma de la ley de creación de e i te be hasta ahora

pero no hemos visto ninguna concreción hay algo de lo que llevamos en esta propuesta de ley que le parezca que no va en sentido de hacer

la independencia la transparencia y la rendición de cuentas en este sentido tampoco compartimos los argumentos que nos ha presentado el gobierno en su dictamen no entendemos por qué hay que esperar a que la ponencia de reforma de e i te be

vemos perfectamente compatible que los trabajos de esta ponencia sean complementarios a los de la reforma de ley que hoy les proponemos por otra parte ya dijimos cuando debatimos y votamos la creación de la ponencia que no nos parecía bien que no se fijaran plazos

es dar respuesta urgente a la demanda ciudadana y a la de los profesionales de e i te be pretender ahora que para reformar la ley haya que esperar a que la ponencia emita un dictamen vuelve a ser otra estrategia de dilación cuyo único objetivo es que nada cambie en el actual modelo de e i te be de hecho han pasado varias semanas desde que se aprobó la creación de la ponencia

por otra parte en el acuerdo que alcanzó el gobierno con el partido popular para la creación de la ponencia no se cita expresamente la reforma de ley de e i te be lo cual es otra muestra
de la absoluta falta de voluntad en este sentido eskerrik asko eskerrik asko martínez jauna aurkako txandarik ez dagoenez

el sentido del voto negativo emitido por mi grupo efectivamente podemos estar de acuerdo con los proponentes que es necesario debatir sobre e i te be y modificar e i te be

porque mientras otras televisiones públicas han realizado reformas integrales han revisado su modelo su estructura su dimensión han tratado de adaptarse a los nuevos retos

en primer lugar también estamos de acuerdo con lo que dice en la exposición de motivos de la proposición presentada que es necesario actualizar su modelo para ponerlo a la altura

audiencias porque no podemos olvidar que estas han ido cayendo mes a mes

el veinticuatro por ciento de audiencia es necesario también modificarla para que sea una televisión de referencia para todos los vascos y las vascas porque en este momento no lo somos para los euskaldunes y mucho menos para los jóvenes y desde luego es necesario una modificación de e i te be para que de verdad responda a los principios de objetividad imparcialidad pluralidad legitimación de nuestro marco institucional y de nuestros marcos de convivencia y de los valores democráticos hemos denunciado en esta tribuna en muchas ocasiones el sesgo político

que tienen no solo los informativos auténticos publirreportajes del gobierno sino el resto de programación del ente ya sean programas de tertulia documentales de humor etcétera lo que circuló por las redes el pasado fin de semana resumen del programa emitido hace un mes es inaceptable en cualquier cadena de televisión pero en un medio público como e i te be debería haber dado lugar a la asunción de responsabilidades y a la dirección y a la dimisión perdón de la dirección del ente en pleno

el menosprecio a españa y a los españoles el insulto a los sentimientos de muchos vascos y vascas que se sienten también españoles y españolas es inconcebible

en una televisión pública como hemos dicho en muchas ocasiones e i te be es una televisión nacionalista para nacionalistas que quiere convertir

hemos dado un paso más ahora también es una cadena que quiere contribuir al menosprecio y al odio a todo lo español por ello consideramos

sobre los principios que deben impulsarla sobre el refuerzo de su carácter de servicio público sobre su organización su funcionamiento su modernización su financiación su transparencia su pluralidad etcétera nosotros planteamos ese debate en esta cámara presentamos una iniciativa al respecto

acordamos entre todos la creación de una ponencia que desde aquí solicito que se constituya cuanto antes porque nosotros no teníamos ninguna intención de dilatar el tema todo lo contrario por ello se tiene que constituir esta ponencia cuanto antes

de la modificación de la ley de creación del ente público por eso nosotros hemos votado en contra de la toma en consideración

porque consideramos que en esa ponencia después del debate conjunto después de la participación aquellos que los grupos consideramos que deben de participar es donde se debe llegar a distintas conclusiones y en su caso a la modificación de la ley de creación de e i te be

no puedan tener representación los grupos parlamentarios que en cuanto a representantes de los vascos y las vascas

se puede realizar a través de esa participación el objetivo es verdad es despolitizar etb es conseguir que etb deje de ser un instrumento al servicio

pero eso no se despolitiza de la manera que propone o que proponía esta iniciativa ni tampoco se consigue con la modificación de la ley de creación del ente porque

lo malo es que esos principios han quedado en papel mojado lo malo es que la dirección del ente

por ello además de la modificación de la ley en esa ponencia debemos tomar medidas para que no ocurra lo que ha ocurrido esta semana y lo que lleva ocurriendo durante demasiado tiempo en e i te be
y por eso desde aquí volvemos a pedir responsabilidades a la dirección nada más muchas gracias eskerrik asko llanos andrea euskal sozialistak romero andrea zurea da hitza

aintzat hartzearen kontra bozkatu dugu y es ahí donde queremos y centraremos el debate en este caso los socialistas también rechazamos toda expresión de sectarismo y desprecio que daña a diferentes sensibilidades y sentimientos sobre todo porque haciendo nuestras las palabras

sino a toda la ciudadanía vasca que se siente vasca y española por eso no se soluciona esto

modificación que mi grupo viene reclamando desde hace años

que hemos votado en contra de la proposición porque la misma además de ser limitada en sus objetivos de reforma

fuera del tiesto creemos que la reforma legal que proponían se ha quedado corta y desfasada porque esta cámara ha abierto la puerta no solo a cambios que nos propone sino a más

por hacer un relato breve en el tiempo el grupo proponente conocía que en noviembre se firmó el acuerdo de gobierno

que poco después el partido popular vio la oportunidad de al amparo de este

integral y así se aprobó e incluso que otros grupos de esta cámara dentro de todo ese debate presentaron sus propuestas para una reforma no corta

integral porque el debate son los problemas de elección composición funciones y atribuciones de la dirección ya se ha dado y creemos por eso que estaba fuera de tiempo y está fuera de tiesto porque nosotros entendemos que esa reforma debe realizarse en la ponencia

pero que no es que no se sepa nada se constituye el día veinte en el seno de la

de la comisión de control de e i te be quiero decir que con leernos la convocatoria ya sabíamos que algún paso ya se había dado sozialistok defendatzen dugu eitbren norabidea

dichos todos los motivos que yo creo que han quedado claro este debate

adecuado nos sentamos el día veinte a hacer el plan de trabajo y si queremos de verdad conseguir lo que todos y todas dijimos

produjo para la creación de la ponencia de reforma integral estaremos de acuerdo en que lo conseguiremos seguro señores proponentes señoras proponentes que nos encontraremos en ese debate

realizado antes por otros grupos y seguro que lo conseguiremos hacer las reformas legales y los consensos para reformar la radio televisión pública vasca

gauzetan oinarrituta bat el debate sobre la reforma integral en esta cámara se sustanció recientemente y la mayoría de la cámara

en un marco de una ponencia resaltaría además que esta decisión se tomó sin ningún voto

dos la ponencia está llamada a iniciar sus trabajos en el seno de la comisión de control de e i te be el próximo veinte de marzo es decir dentro de diez días por tanto ningún ánimo de dilación sino todo lo contrario para comenzar los trabajos inmediatamente ese veinte de marzo como digo dentro de diez días tres uno de los aspectos que debemos de tratar en ese debate para la reforma integral es indudablemente el marco legal pero no solamente en la reforma parcial del ochenta y dos como se proponía sino

de todo el marco normativo y sus consecuencias en el modelo de servicio audiovisual público que queremos que tenemos y que queremos esto es

de la ley general de comunicación audiovisual de la ley de mil novecientos ochenta y dos de creación de e i te be de la ley seis barra dos mil doce de flexibilización de gestión de las televisiones autonómicas

normativos y legales que nos afectan pero además nuestro objetivo es conseguir como aquí se ha dicho también una televisión de calidad una televisión transparente una televisión independiente

tres factores fundamentales y no todos dependen de la e i te be la cultura democrática de la sociedad es también fundamental para que consigamos tener un servicio audiovisual público de calidad la estabilidad de la financiación de la que ya hablé en el anterior debate y no voy a volver

los contrapesos internos de gobernanza necesarios en cualquier ente y más público beraz

para cualquier gobierno y una prioridad para este gobierno para el gobierno vasco pero como constatamos en el anterior

la interpelación a la consejera artolazabal vimos obviamente que no es una prioridad para este gobierno y tenemos muchas dudas al respecto recordé el otro día en mi intervención un informe muy ilustrativo de la situación de las familias en la comunidad autónoma del país vasco del ararteko

en euskadi análisis y propuestas desde luego estos datos y además es un informe reciente tienen que llevarnos a la reflexión

es que siendo este informe del año dos mil catorce este ejecutivo no haya tomado

porque además tenemos que decir que en este ámbito de las ayudas a la familia el ejecutivo comenzó con muy mal pie cuando conocimos en el dos mil catorce que se

a las familias en el presupuesto a la mitad bajó la partida

y luego además se dictó una resolución específica

de febrero quedaron sin atender a eso hay que sumarle también que este gobierno murrizketa gehiago egin dituela

tenemos que decir claramente que se han consolidado con el gobierno del partido nacionalista vasco ese recorte del siete por ciento en la disposición adicional de los sucesivos presupuestos la legislatura pasada sí tenemos que decir que la disposición

la reducción se refiere a todas cuantías presupuestadas se expresa específicamente en el apartado dos las ayudas a la conciliación y entendemos además que ese

sigue puesto que la disposición adicional séptima se habla que

durante el ejercicio dos mil diecisiete la cuantía de la renta de garantía de ingresos en cualquiera de sus modalidades

la subida del uno coma cinco se hace respecto a la bajada en la cuantía del siete por ciento es decir

en los mismos términos que se recortaron en la anterior legislatura por eso hablamos claramente

de los recortes con el gobierno de urkullu también en esta legislatura cuando hablamos de políticas

principales instituciones que tenemos sí que es cierto que tenemos distintos modelos con sus propias peculiaridades tenemos hablar de diseñar políticas integrales de apoyo

públicos entre ellas están las medidas de carácter económico medidas además que en el informe del ararteko al que he hecho referencia anteriormente se hace una referencia muy especial a estas medidas

muy claro y muy directo en el incremento de la natalidad sobre todo se hace referencia al impacto que tiene en el incremento de las cifras de natalidad las ayudas a la conciliación y se hacen estudios comparativos con las experiencias en otros países de la unión

en euskadi tenemos un problema de natalidad muy importante estamos en una de las sociedades más envejecidas no solo del resto de españa sino de europa estamos con

se emancipan así el diecisiete por ciento de las familias con un cabeza menor de treinta y cinco años

y las tasas de emancipación son más retrasadas que en otros lugares

un treinta por ciento e incluso ese porcentaje a veces llega a un cuarenta por ciento de las personas jóvenes que no han comenzado a tener un proyecto de vida

el partido popular viendo los datos constatados los hechos de este gobierno vemos claramente que no se ha avanzado en política

a los hechos nos remitimos he hecho referencia al recorte en las ayudas a la conciliación he hecho referencia a los recortes en las cuantías contemplados en las disposiciones

que se ha remitido en esta legislatura en este primer año

haciendo referencia con estos datos al incumplimiento de las previsiones del propio

su evaluación estamos hablando por otra parte de que no se ha remitido el cuarto plan

de esa inversión plurianual que nos prometió el lehendakari por marzo en periodo de precampaña electoral se habló concretamente de una estrategia

pero lo relevante en las palabras del lehendakari es que no se hablaba de una estrategia de apoyo a la familia y a la infancia sino que esa estrategia iba acompañada de un

de euros más de los que había hasta ese momento

no hemos visto nada ni siquiera una ínfima parte de esos millónes que nos anunciaba el señor lehendakari por otra parte también vemos y percibimos una

toña en relación a una interpelación que también le formulamos la legislatura pasada

que no se iba a remitir el cuarto plan de familia porque se iba a remitir pero dentro

más ambiciosa esa estrategia de infancia y familia

incluso se hablaba de un borrador y no conocemos nada de ese borrador y por otra parte tengo que decir que

parlamentaria del partido nacionalista vasco a propósito de otro debate pero que también tiene que ver con políticas de familia y conciliación como son los permisos y que vamos a tener luego

de la sesión de hoy hablaba que tal y como adelantó

esto se dijo el veinticinco de febrero del año pasado próximamente se presentará la estrategia principal en relación

que está elaborando el gobierno sobre este tema es decir el gobierno ha anunciado cuestiones en relación a las

recortes que he repasado que no han llegado a esta cámara y de las que no tenemos noticia sí que es cierto que la consejera tanto en la primera comparecencia al explicar las líneas generales del departamento como

se ha concretado a la hora de ver el acuerdo de gobierno y ver el programa de gobierno para la presente legislatura entre el partido socialista y el partido nacionalista vasco que se limitan a incrementar en un cincuenta por ciento

a familias con hijos e hijas extendiéndola progresivamente de dos a tres años las ayudas económicas por el segundo hijo es decir este es el programa este es el compromiso el único compromiso que vemos de este gobierno en relación a las políticas de familia tenemos que decir que tampoco tenemos mucha credibilidad en este gobierno cuando nos está anunciando esa estrategia de familia de la que hay un borrador que la anuncia el lehendakari en el pleno de política general del año

es decir tampoco tenemos mucha credibilidad y mucha confianza en un gobierno

en un acuerdo de gobierno porque ya vemos que también muchas veces las palabras de este gobierno se las lleva el viento en cualquier caso estas ayudas y este compromiso de este incremento del cincuenta por ciento para nosotros eso es insuficiente creemos que hay que ir mucho más allá

en principio en eliminar esa disminución de la cuantía del siete por ciento que va en la disposición adicional y que se refiere a las ayudas por nacimiento por

a la conciliación por eso y haciendo ya un repaso y plasmándolo

para volver a reivindicar las cuestiones que hemos solicitado en reiteradas ocasiones a este ejecutivo volvemos a instar en una moción a que el gobierno vasco remita la evaluación de ese tercero plan interinstitucional de apoyo a las familias es necesario tener la

plan interinstitucional de apoyo a las familias que además muchos de los aspectos han sido incumplidos

a ver también los incumplimientos del gobierno vasco y no solo eso sino también para la elaboración de ese nuevo plan que va ir

y la infancia del que se supone que había un borrador pero como digo se debió de perder en el traspaso de poderes y por otra parte en un tercer punto hablamos de incrementar el presupuesto destinado a las políticas de familia

y con las ayudas económicas por hijo y por conciliación en relación a las enmiendas presentadas y voy acabando señora presidenta

puntos planteados por la enmienda de elkarrekin podemos podemos coincidir sobre todo porque algunos puntos son

que nosotros planteábamos nuestra iniciativa pero nos hubiera gustado una mayor concreción en cuanto al incremento de las ayudas a las familias las ayudas económicas que no hemos visto en la enmienda en cualquier caso yo también

al diálogo y a continuar las conversaciones que también hemos iniciado

los dos partidos que apoyan y sustentan que apoyan al gobierno también decir que

como es la remisión del cuarto plan dentro de esa estrategia así que es cierto que nosotros hablamos de este periodo de sesión es

poner remitir esta estrategia pero ustedes han omitido dicho plazo y se han remitido a señalar a la mayor brevedad posible y en el tercer punto que es el compromiso

pues tenemos que decir que nos parece insuficiente sobre todo porque hablan de incrementar el cincuenta por ciento de las ayudas con hijos e hijas extendiéndolo progresivamente de dos a tres años

y únicamente para el segundo hijo y ya les décimos señores del partido nacionalista vasco

pues no tenemos mucha confianza en que vayan a cumplir esta previsión porque tengo que decir que muchos de los anuncios y de las previsiones y de los compromisos que ha adquirido este gobierno en relación

grupos y a ver si puede haber un acercamiento en la línea de ir un poco más allá o bastante más allá

eskerrik asko egun on denoi voy a explicar la posición de nuestro grupo político

y porqué finalmente hemos llegado a un acuerdo con el grupo de eh bildu y yo creo que la señora garrido va a entender porqué no podíamos llegar a un acuerdo con ellos y porqué tampoco con el gobierno para nuestro grupo las políticas destinadas a las familias

casi exclusivamente en torno a las ayudas económicas en una sociedad sobre todo caracterizada por la desigualdad

la desigualdad económico y social y la desigualdad de género y décimos esto porque siendo partidarios y esto me gustaría dejarlo claro desde el principio

de que existan ayudas a las familias tanto por nacimiento adopción como especialmente las destinadas a la conciliación vemos con peligro los planteamientos que reducen la política

sin pretender abordar realmente las causas que motivan que muchas familias no puedan desarrollarse

y otras las menos sí que puedan hacerlo y tanto la justificación de la interpelación que motiva esta moción

como en el debate que la señora garrido tuvo con la señora artolazabal nos parece que al final la cuestión se reducía y hoy lo constatamos

y para nosotros el debate sobre las políticas de apoyo a las familias no puede acabar siendo el debate sobre las cuantías a las ayudas concretas por muy importante que estas ayudas sean creo que en el diagnóstico que hacemos del país y por lo tanto en el diagnóstico que hacemos de las familias no coincidimos pero tampoco coincidimos

frente a aquellos que pretenden incidir en la natalidad con políticas en torno a cheques regalo

que solo haciendo una política pública dirigida a cubrir las necesidades y los derechos de la gente podremos abordar realmente la política de apoyo a las familias y por lo tanto abordar también el tema de la natalidad el problema

hijas e hijos en un mundo donde la población sigue en aumento además el problema es que en euskadi la mayoría de jóvenes

económicas y laborales porque también se ha dicho aquí que por no poder atender a los hijos

por la cuestión del trabajo por la contradicción capital

por mucho que tengamos ayudas de cuatrocientos de quinientos o de mil euros a lo cual como digo no nos oponemos

el problema ni va atajar las verdaderas cuestiones por las que no se tienen hijos no va a solucionar si no tenemos acceso a la vivienda no lo va a solucionar

en el que no sabes si seguirás dentro de nueve meses no lo va a solucionar si sabes que al coger la reducción por cuidado de un hijo vas a tener problemas en el trabajo o incluso te van a despedir y no se va a solucionar si son incompatibles los horarios de trabajo con los horarios escolares no se soluciona sin una educación pública y gratuita de calidad los cero años y en este punto quería aprovechar para mostrar el apoyo y la solidaridad de nuestro grupo político de nuestro grupo parlamentario con aquellas y aquellos que hoy se están manifestando se están movilizando en todo el estado por una educación como la que yo describo pública gratuita y de calidad desde los cero años y desde luego no abordaremos eficazmente una política de apoyo a las familias si al final todas las medidas que aprobamos acaban siendo absolutamente ineficaces

de la que ayer ocho de marzo hablaban todos los periódicos que es la mujer la que concilia

acaba asumiendo la práctica totalidad de las labores de reproducción de cuidados y del hogar creemos por lo tanto que hay que incidir en los derechos laborales

por las empresas podremos dar seguridad a quien quiera tener descendencia adoptarla o acogerla y esto no lo tendremos no lo podremos hacer mientras las políticas de empleo se limiten como se limitan ahora a fomentar desde fuera la creación de empleo

entre empresarios y trabajadores incluso aunque se consiga reducir el ejército de reserva por debajo del diez por ciento como se propone el gobierno vasco

del mercado de trabajo es verdad que luego se va a dar un debate sobre los permisos de maternidad y paternidad y por lo tanto yo no quiero

es verdad también que deberíamos reducir los horarios de trabajo ordinarios sin reducción salarial porque si no la conciliación no será posible tampoco podremos abordar una política de apoyo a las familias si no hablamos de vivienda

un objeto de mercado y no un objeto de primera necesidad y hoy en día aun con todo lo que se ha ya hecho sigue siendo así

podremos tener un futuro de responsabilidades compartidas en el hogar y esto es imposible de hacer mientras las niñas y los niños vean a la salida del cole casi siempre mujeres en reducción de jornada muchas veces y en cambio a su padre como el que vuelve del trabajo al final de la tarde cuando ya se han hecho los deberes

en una educación pública gratuita desde los cero años y en espacios públicos donde poder atender a la infancia solo incrementando también la red de atención a las personas de la tercera edad podremos cubrir la necesidad de su asistencia sin que la misma recaiga como pasa hoy en día fundamentalmente en las mujeres

y todas ellas tienen una raíz común una mayor implicación desde lo público un sector público potente y un cambio radical en los derechos laborales y sociales

creemos que algunas de estas cosas nos separan de algunos de ustedes en especial de quienes presentan esta moción pero creemos que también del gobierno mientras algunos hablan de rebajas fiscales nosotros creemos que para poder cubrir estas necesidades hace falta incrementar la presión fiscal

solo con una fiscalidad mejor y realmente distributiva se podrán garantizar los ingresos suficientes

las necesidades algunos nos dirán que no es una cuestión cuantitativa de cuánto invertir y yo estoy de acuerdo

pero es verdad que también que alguna mayor inversión esas políticas podrán llegar a mejor puerto y es verdad que el ararteko ha dicho que estamos lejos de las medias europeas a las que pretendemos llegar por ello cuando hablamos de políticas de apoyo a las familias en nuestra opinión debemos de hablar de políticas de empleo debemos de hablar de políticas de vivienda de política de educación

de una política muy importante para esta cuestión la atención a la diversidad y también sobre todo de una política fundamental para esta cuestión la política de igualdad nuestra transacción y nuestra enmienda original está pensada desde este punto de vista y aun siendo abierta

que le ponga unos deberes fáciles al gobierno que es lo que pensamos que ha hecho el partido popular al hablarle solo de cuantías económicas nosotros queremos políticas diferentes

la prueba de que el partido popular no está impugnando las políticas que hace el gobierno es que finalmente las dos iniciativas que plantean son muy parecidas

no nos oponemos pero que nos parece que no son la centralidad del debate para nosotros la centralidad del debate tiene que ser hacer unas políticas públicas generales

por lo tanto sin menoscabo de las cantidades que se deban destinar a las prestaciones y a las ayudas añade algunas cosas importantes la lucha contra los recortes en esta materia

más vulnerables y sobre todo creemos la impugnación a las políticas actuales tratamos de marcar con nuestra iniciativa o contrainiciativa algunas características fundamentales para la elaboración de las políticas llamadas de apoyo a las familias para que el gobierno no tenga las manos libres para hacer lo que él quiera

y derechos e intervención en el mercado laboral frente a precariedad desigualdad y desigualdad de género eskerrik asko eskerrik asko hernández jauna

muchas gracias presidenta los socialistas reconocemos la importancia de las familias como núcleo de la relación humana y de educación social afectiva y comunitaria y por ello apostamos decididamente por el desarrollo de políticas que faciliten a las personas con responsabilidades familiares

la realización de su proyecto vital en las mejores condiciones posibles ninguna persona está obligada a emprender un proyecto familiar

a un proyecto de iniciar una familia por razones económicas o laborales

para poder tener a sus hijos la iniciativa hace referencia a recortes en las ayudas a las familias sin embargo durante los años dos mil quince dos mil dieciséis y dos mil diecisiete

a cabo dichos recortes como afirma la señora garrido

de recortes cuando ya están cincuenta millónes a disposición de las familias para acogerse a estas ayudas que es más de lo que se disponía hasta ahora y que además coincide con que hemos sabido que en el área de ayudas a la conciliación no se ha agotado

dar dinero a ayudas solamente no fomenta la natalidad yo estoy de acuerdo con ello con el señor hernández y con la señora

de lo que hablamos nos da la razón a quienes venimos insistiendo en que nuestro modelo de protección social y nuestras propuestas para favorecer la maternidad deben ir mucho más allá de las ayudas lo que facilitará a las mujeres tomar la libre decisión de ser madres tiene mucho más que ver con la calidad de su

de la flexibilización de las jornadas de trabajo adaptadas a esa necesidad de poder contar

de que en las negociaciones colectivas incluya este factor como elemento esencial el pp quiere hacer creer lo que no es que hay recortes en contra de toda evidencia presupuestaria

y que se mantuvieron durante el año dos mil catorce dado que para ese año se recortó el presupuesto

que se habían venido aprobando presupuestariamente hasta ese momento y que se corrigió después de iniciativas que se trajeron aquí a este

que se hicieron entre los partidos a la hora de llegar a acuerdo en los presupuestos del año dos mil quince de esta forma para el año dos mil quince ya la partida fue de treinta y uno mil trescientos setenta y siete millónes de euros

millónes de euros y para el dos mil diecisiete de treinta y dos coma cinco también millónes de euros las ayudas a la conciliación que concede el gobierno vasco a las familias que se acogen a una reducción de jornada o excedencia para el cuidado de hijos menores de doce años o de familiares dependientes recuperaron

previo a la crisis y ello a pesar de que se ha producido una disminución de la demanda de dichas ayudas el departamento de empleo y políticas sociales abonó

en el año dos mil dieciséis con un gasto de treinta y dos millónes de euros dicho presupuesto

dado que la cuantía que se había presupuestado era de treinta y dos coma cinco millónes en total el sesenta y cinco por ciento de ellas se correspondieron a familias con ingresos

equivalentes a unos cuarenta y dos mil euros anuales en caso de un matrimonio con dos hijos

para contratar a un cuidador para los hijos con apenas cuatrocientos solicitudes a propuesta de la consejera de empleo y políticas sociales la señora artolazabal el consejo de gobierno del martes pasado del siete de marzo ha aprobado una partida de veintisiete coma cincuenta y siete millónes de euros para financiar el programa de ayudas

e hijas lo que da cuenta de la voluntad de este ejecutivo de dar protección y apoyo a las familias y además para el año dos mil diecisiete se ha presupuestado treinta y dos coma cinco millónes para la conciliación

no podemos hablar por tanto de recortes este año en estas ayudas debemos tener en cuenta la modificación introducida no obstante en el dos mil quince el criterio de nivel de renta que se introdujo ese año y que pondera la renta familiar según el número de miembros

en una reforma que también se aplicó a las ayudas por nacimiento de hijo la prestación principal que se concede a las familias en euskadi estas ayudas son un derecho subjetivo al cual se accede por el mero hecho de cumplir los requisitos exigidos

a la conciliación en cambio no están sujetas a presupuesto de forma resumida el gobierno vasco optó por mantener las cuantías a las rentas más bajas y redujo el montante de las prestaciones a los hogares de ingresos medios o altos el balance de dos mil dieciséis en lo que respecta a las ayudas de conciliación

pero tiene una explicación en realidad la demanda real sigue baja en un contexto todavía de baja natalidad y que se ve agravado también por los efectos

que ha conseguido un incremento en los contratos a tiempo parcial se ha conseguido una reducción de jornadas y salarios

eso ha generado también que se produzca una disminución en las cantidades que se reciben a las ayudas porque las ayudas se calculan también en proporción

la administración tiene seis meses de plazo para abonar las ayudas jurídicamente es importante tener en cuenta que en el año dos mil dieciséis se pagaron trece mil expedientes que quedaron pendientes del dos mil quince por lo que las solicitudes efectuadas estrictamente a lo largo de este año quedaron en dieciocho mil quedan cinco mil novecientos del último trimestre que se abonarán dentro del presupuesto del año

nosotros consideramos como ya he dicho que las ayudas son importantes sí pero hay que ir mucho más allá por eso

vamos a votar a favor de nuestra enmienda a la totalidad la enmienda que firmamos

hemos estado hasta el último momento intentando firmar una enmienda transaccional con el partido

que nos pudiéramos acercar a lo mejor a las posturas que mantenían

de elkarrekin podemos que no estaban muy alejadas de lo que nosotros habíamos planteado pero

nos habíamos comprometido y en el último segundo el partido popular ha decidido que no firmaba da igual nosotros creemos que era importante lo que recogíamos en nuestra enmienda a la totalidad que además no se diferenciaba mucho de lo que había planteado el grupo popular por lo tanto no entendemos por qué no se ha podido hacer

lo conseguido con esta negociación es que no saldrá

ninguna de las propuestas que en este punto se han traído hoy a esta cámara espero todavía tenemos tiempo porque vamos a seguir hablando de conciliación en el punto sexto del orden del día

de poder sacar algo que mejore también las políticas en materia de familia y en materia de conciliación porque yo creo que

todos los grupos políticos y yo lo que creo señora garrido que usted ha venido con una iniciativa para hacer creer que el partido popular

en cuanto a las ayudas que se recogen presupuestariamente no han sido recortadas en el presupuesto de este año pero luego a la hora de negociar ha enredado ha enredado ha enredado y lo único que ha conseguido al final es que no salga hoy de aquí absolutamente nada porque ha impedido con ese planteamiento podríamos haber negociado con más tiempo a lo mejor algo que hubiera salido firmado por todos los grupos y lo que es de justicia hay que decirlo y yo lo digo ahora mismo aquí lo siento siento que al final después de estar hablando

de nuestros planteamientos porque todos hemos coincidido en el fondo de lo que hemos hablado y aportado hoy ahora mismo pues no hayamos podido llegar a un acuerdo en algo tan importante como son las políticas de ayuda a las familias vascas que creo que en este momento

por los recortes de una reforma laboral que ha conseguido una reducción de salarios que ha conseguido reducciones de jornadas que ha incrementado las contrataciones temporales y que al final toda esa suma lo que hace es

pueden pedir al gobierno vasco sean menores porque se calculan también en relación a las mismas pues no hayamos podido conseguir también alguna enmienda transaccional que pueda servir que pueda aportar para avanzar como era la enmienda transaccional que nosotros traíamos que sí avanzaba en esta línea que sí traía unos compromisos y a los cuales voy a hacer referencia porque ya no me da tiempo

gracias señora presidenta pues mire señora sánchez diálogo la verdad es que casi

pleno del parlamento vasco ha coincidido que varios parlamentarios llevamos varios puntos y si algo ha habido a lo largo sobre todo del día de ayer ha sido intercambio de llamadas e incluso

con usted en la mesa en este tema no he hablado mucho con usted porque ha sido

le corresponde la responsabilidad y el adquirir los compromisos es al departamento ustedes tienen lo que tienen en este gobierno qué le vamos a hacer pero le corresponde al departamento de empleo y políticas sociales y por eso la interlocución

más directa con el partido nacionalista vasco en este caso y le decía que hemos estado sentados hasta esta misma mañana por lo tanto yo creo que esfuerzos por llegar a acuerdos se han hecho muchos incluso yo le insto que si quiere hacer un nuevo esfuerzo pues hacemos un nuevo receso por nuestra parte

que cuando sube a esta tribuna pues no se dedica usted a fijar una posición más allá de decir que lo que dice el partido popular

las he sustentado en hechos concretos y es más es que además hasta esta legislatura en la que ustedes han entrado en el gobierno con el partido

es que coincidíamos en denunciar y denunciamos y llegamos a acuerdos para denunciar la rebaja del presupuesto a la mitad

es que coincidíamos y ustedes denunciaron la pasada legislatura tanto usted como la señora sarasua la rebaja de la cuantía del siete por ciento en las disposiciones adicionales

en muchos de los recortes que se han puesto en marcha

partícipes de un gobierno que me parece muy bien por ustedes por aquello que han podido conseguir estando en el gobierno pero quiero decir que al final lo que hay que ver es si eso es beneficioso para los ciudadanos vascos y al final ustedes han tenido que tragar también recortes que se están consolidando mire cuando me habla de incremento de las ayudas pues claro que sí es que las solicitudes pueden marcar una demanda concreta pero si incrementáramos las cuantías de las ayudas desde luego el presupuesto

por eso este grupo es defensor de incrementar de las ayudas las ayudas la cuantía de las ayudas esas que ustedes y le tengo que recordar que en la disposición

se habla claramente de rebajar las cuantías en un siete por ciento y afecta a dos ayudas a las ayudas por nacimiento y a las ayudas por conciliación es la misma disposición adicional que venía

anteriores y que también viene en este presupuesto que ustedes son corresponsables porque forman parte del gobierno pero luego por otra parte me ha llamado también la atención que usted juegue tanto a pitonisa y que a futuribles

coherente y más vale en este caso pájaro

va a ser la de la abstención es decir nos parece que los acuerdos alcanzados son insuficientes porque a nosotros nos hubiera gustado llegar mucho más allá

en las cuantías y el incremento de las cuantías pero bueno más vale algo que nada y ustedes por lo menos en su enmienda

del equipo de gobierno eso sí tengo que recalcar que para el grupo popular nos parece insuficiente pero mire como tampoco tenemos mucha confianza en el cumplimiento de los compromisos por parte de este gobierno porque yo creo que ya llueve sobre mojado en esta materia pues bueno ya lo tenemos

programa de gobierno tenemos el compromiso del incremento del cincuenta por ciento y parece ser que con nuestra abstención también va a salir ese incremento del cincuenta por ciento bienvenido sea

creo que hemos reivindicado no solo yo hoy en esta tribuna sino también en anteriores ocasiones y en la legislatura anterior la remisión

y les he dicho y especialmente al partido nacionalista vasco nos anunciaban que existía un borrador pero que no lo conocemos que se ha debido de perder en el traspaso de poderes y por otra parte pedíamos ya insistentemente la igualación de ese tercero plan de familia por lo tanto

y tener una política posibilista y sobre todo va a estar allá en donde se aprueben medidas que aunque no sean

de alguna forma pueden beneficiar a las familias vascas como puede ser en este caso besterik ez eskerrik asko eskerrik asko garrido andrea elkarrekin podemos hernández jauna zurea da hitza

casi todos coinciden pero como ha dicho la señora sánchez no va a salir nada yo tengo una solución pueden ustedes votar

vayan a votarnos a nosotros lo digo porque es que las cosas que ustedes han dicho aquí

en esa transacción es que lo ponen y en las otras dos iniciativas no lo ponen hoy aquí tenemos tres iniciativas ha habido al menos cuatro grupos que más o menos han explicado aquí que están de acuerdo en una serie de cosas

están solo en una de las tres iniciativas que se presentan hubiera sido mejor que lo hubiéramos hecho todos mejor y que hubiéramos llegado a un acuerdo previo bueno claro sí bien

podemos votar desde luego nuestro grupo no lo digo con sorna yo les animo a votarlo y además no lo veríamos como una derrota del gobierno sino como un éxito de unas políticas concretas que parece que todo el mundo

seguramente será porque en el fondo no estamos tan de acuerdo esa es al menos mi opinión la iniciativa que presenta el gobierno y la iniciativa que presenta el partido popular y además lo ha dicho alguien más también en esta tribuna no lo digo yo solo

hablan de un par de cosas que también décimos nosotros respecto a valorar el plan anterior traer un nuevo plan de una manera o de otra y luego hablan

no puede ser solo el de las cuantías para estos dos tipos de ayudas concretas aunque luego

mucho en eso pero es verdad que también han dicho efectivamente que no se conforman o que no están de acuerdo con que las políticas de apoyo a las familias

en nuestra transacción nosotros pensamos que nuestra iniciativa es mejor

al gobierno las otras dos iniciativas no marcan hoja de ruta más allá de sí bueno que se traiga un plan claro pero no enmarcan una hoja de ruta de hacia dónde queremos ir

nosotros constatamos que según lo que dicen parece que quiere ir en esa misma dirección en la que nosotros también estamos

las otras dos la de la señora garrido y la de pnv y partido socialista no marcan hoja de ruta tienen tres puntos pero no marcan una hoja de ruta de cómo queremos que sean las políticas de ayudas dicen haremos un plan valoraremos el plan anterior

en los presupuestos algo que como se ha dicho aquí también venía en el acuerdo de gobierno es decir además el gobierno

se puede negociar o se puede pedir apoyos yo de verdad con lo que he oído estoy muy sorprendido porque yo creo que luego las políticas

al partido socialista y al pnv no van en esta dirección de lo que se ha dicho aquí pero bueno yo

de esas políticas integrales que no están solo en torno a determinadas ayudas económicas sino una sociedad que es profundamente desigual pues hay una iniciativa concreta que marca una hoja de ruta al gobierno para ir en esa dirección

y hay una cosita que ha comentado la señora sánchez que

porque se ha referido a que ninguna mujer debe renunciar a emprender su trayectoria profesional y también se ha referido a las madres pero entiendo que ha sido un pequeño lapsus porque entiendo que comparte con nosotras y con la mayoría de este parlamento de que este tema

y de mujeres no solo de mujeres lo cual me parece que son pequeñas cosas que tenemos que ir reparando porque conciliar

solo las mujeres y con respecto a los recortes murrizketak egon diren edo ez nik uste dut

con ayudas de emergencia social no creo que se solucionen las situaciones que son estructurales de las familias vascas que están pasando situaciones

bueno señora garrido si a usted

el hablar cinco veces por teléfono el mandarse tres correos electrónicos

por negociar dice no yo lo he llevado con el partido nacionalista yo con usted

que se ha perdido mi llamada por el camino pero desde luego he hecho todo el esfuerzo hasta el último segundo por intentar cerrar esa enmienda transaccional que

en el último segundo como he dicho ha dicho y ha declinado firmar nosotros teníamos un compromiso de firmarlo con usted y lo hemos mantenido

pues por supuesto que lo siento me alegro que por lo menos haya rectificado y piense que y vayan

en el día de hoy pueda salir la enmienda a la totalidad que hemos firmado el grupo nacionalista vasco y el grupo socialista porque eso es bueno y además

a la que usted había planteado los matices eran muy pequeños pero no ha hecho el esfuerzo de poder llegar a firmar esa enmienda transaccional

evidentemente las circunstancias han cambiado desde el año dos mil catorce aquí ya se lo he explicado perfectamente con cifras en mi primera intervención y la iniciativa en el parlamento la trajimos nosotros aquí a finales

y salió aprobada la necesidad de que se incrementaran esas partidas presupuestarias para las ayudas a la conciliación y luego se recogió ese incremento ya porque estábamos a punto

se corrigieron esas partidas y se incrementaron con lo cual evidentemente que mi grupo parlamentario los socialistas vascos hicimos un esfuerzo muy importante

comprometidos en exigir ese incremento de las ayudas señor hernández yo le invito a usted a que su grupo

a favor de la enmienda a la totalidad que hemos firmado el grupo nacionalista y el grupo socialista porque así podrá salir esa enmienda

recoge como voy a explicar ahora cosas importantes y que servirán para dar un paso adelante en estas materias que es lo importante

por supuesto que todas estas cuestiones y la conciliación

eso en su totalidad esta sociedad no avanzará lo que tiene que avanzar en la corresponsabilidad pero mi referencia

lo que sí es una realidad que casi el noventa por ciento de las ayudas que se siguen pidiendo las hacen las mujeres

hoy en día y sigue recayendo hoy en día

la conciliación en las familias y eso es lo que tenemos

en ese tema y ahí no vamos a discrepar nunca y

rápidamente porque si no se me va a acabar el tiempo la enmienda a la totalidad a la que hemos llegado el grupo nacionalista vasco y el grupo socialista

recoge que es importante efectuar en los próximos dos meses la evaluación del tercer plan interinstitucional de apoyo a las familias como recogía la iniciativa del partido popular en segundo lugar el parlamento insta al gobierno vasco a elaborar y remitir a la mayor brevedad posible la estrategia

interinstitucional de apoyo a las familias dos mil diecisiete dos mil veintiuno donde han de figurar las líneas estratégicas de actuación en las medidas a desarrollar

extendiendo progresivamente de dos a tres años las ayudas creo que este es un paso importante

al igual que para el grupo nacionalista en el acuerdo de gobierno ya recogíamos nuestro compromiso de promover una estrategia

de una sociedad vasca a través de políticas de apoyo a las familias y a la infancia

y medidas efectivas en el campo de corresponsabilidad y conciliación también la necesidad de

y formación la necesidad también de adaptación de los horarios laborales de los padres a los servicios de guarderías de haurreskolas también la necesidad de promover

y fomento de planes de flexibilización del horario de trabajo que incorporen en su modelo organizativo
para conseguir que las madres amaitzen joan

más bajos seguimos teniendo ingresos más bajos que los hombres puedan

una conciliación que ahora mismo la situación actual no le permite es por ello por lo que vamos a votar a favor de nuestra enmienda

gutxienean nabartzeko señora garrido una cuestión previa mire

las políticas de familia son de una relevancia altísima porque en ello nos estamos jugando muchas cosas entre ellas

el futuro y las políticas de bienestar no me gusta entrar a este tipo de debates del tú más

quién apoyó quién apoyaba al gobierno cuando se aprobó la reducción del siete por ciento que hoy aparece en la sexta disposición adicional y mire usted hablaba

no sé qué marcos mire yo creo que para estas alturas deberían ir cogiéndole un poco el tranquillo al lehendakari y debería de darse cuenta de que

que suela prometer lo que no puede cumplir y anunciando las cosas con solemnidad como las anuncia tampoco anuncia nada en lo que no cree o en lo que no cree estrictamente necesario

de las distintas enmiendas bueno yo creo la nuestra

recogía literalmente su primer punto concretaba y matizaba el segundo ya que entre otras cosas usted pedía que la estrategia incluyera el cuarto plan interinstitucional y nosotros

que había sobre todo de derivar el cuarto plan interinstitucional la estrategia y creo que mejoraba el tercer punto a pesar de que

no le ha gustado mucho no sé quién de los intervinientes ha dicho

que no hemos dicho nada diferente a la señora artolazabal bueno yo no sé lo que ustedes esperaban no sé si ustedes esperaban

direla decía el señor hernández una cosa que también ha formado parte

no se puede arreglar no se puede arreglar si no es con unas estrategias integrales unas estrategias integrales una estrategia integral

que habrá de tener tres características principales la primera habrá de ser sostenida en el tiempo esto no se resuelve en un ejercicio presupuestario en una legislatura probablemente

el esfuerzo para ser sostenido en el tiempo habrá de ser sostenible económicamente y eso requiere de un gran acuerdo interinstitucional

en este país se habla de economía también hay que hablar principalmente con las diputaciones forales y habrá de ser sobre todo un esfuerzo compartido compartido por todos los agentes políticos económicos sociales donde la conciliación

es un eje central y donde por ejemplo otro eje central pueden ser las guarderías y tantos otros de servicios públicos que todos consideramos esenciales por lo tanto probablemente hoy hemos perdido una oportunidad hemos perdido una batalla

amplio que es lo que necesita esta materia para dar la vuelta a esa tasa de natalidad con la que nos seguimos jugando el futuro y el estado del bienestar

también hemos puesto ciertos precedentes en que en un futuro no muy lejano va a ser posible que acordemos conjuntamente
este tipo de políticas eskerrik asko eskerrik asko urrutia jauna

hauek somos conscientes del trabajo que vienen realizando las diputaciones forales en la lucha contra el fraude fiscal y de la importancia que ha tenido por ejemplo

no solo desde diferentes fuerzas políticas incluida euskal herria bildu por supuesto sino por parte de los propios inspectores de hacienda

son los que están en el día a día de esta lucha contra el fraude

pero ello no es óbice para que creamos que para la lucha contra el fraude

herramientas porque con el intercambio de datos con el trabajo de gestión

son siempre sobre personas que ya están controladas y por desgracia lo que se consigue con la investigación con el trabajo real de inspección no es tan abultado y es por medio de esta de la inspección por donde se llega a aquellos

por las haciendas debemos de dotarnos de todas aquellas herramientas que no solo nos permitan detectar el fraude ya perpetrado sino que nos permitan prevenirlo

evitarlo se trata de conocer el máximo posible en relación al fraude porque solo así podremos enfrentarnos a él es necesario poder hacer un estudio continuado de la evolución del fraude para llegar a identificar sus causas y la mejor forma de combatirlo

el fraude y actuar contra él es conocer los entornos o actividades más proclives a ello las vías y métodos más utilizados y en definitiva

del fraude y cómo prevenirlo porque la realidad es que queda mucho camino por hacer el año pasado conocimos el estudio sobre economía sumergida y fraude que realizaron los profesores de la upv gallastegui zubiri

y las conclusiones de ese estudio son esclarecedoras

es decir más de un diecisiete por ciento del producto interior bruto se mueve anualmente en este país en economía sumergida

millónes de euros anuales de los que más de dos mil son los que dejan de recaudar las haciendas vascas

la cosa no queda ahí la cosa no queda ahí porque los propios profesores reconocieron

ya que las herramientas utilizadas eran de menor potencia de lo que hubieran querido y los datos de los que dispusieron no eran suficientes además subrayaron la imposibilidad de conocer y medir

o el ocultamiento de bienes en los tan famosos paraísos fiscales iruzurraren inguruko datuei dagokiola argitasuna

uko egin zergatik ez dugu aukera hau hartzen zergatik ez diogu lanari ekiten de verdad si queremos luchar contra el fraude fiscal si queremos que la ciudadanía se tome en serio la lucha que contra el fraude fiscal están haciendo las instituciones crear el observatorio independiente sería un paso importante sería un paso de gigante porque si queremos ser creíbles ante la sociedad

reales debemos tener datos contrastables tenemos que poner medidas preventivas tenemos que conocer las experiencias de otros países para poder implantarlas aquí en definitiva la sociedad tiene que percibir que se hace todo en contra del fraude algo que lamentablemente hoy en día no está ocurriendo porque no podemos contentarnos con tener cifras de fraude algo inferiores a las del estado porque junto a una política fiscal audaz la lucha contra el fraude puede dotarnos

de más recursos para activar políticas públicas en favor del desarrollo de la sociedad y de nuestra economía porque si queremos ser más efectivos en la lucha contra el fraude hay que tener todas las herramientas activas

esa ciudadanía que paga religiosamente sus impuestos harta de ver cómo algunos se lo llevan crudo y no solo no hacen la aportación que debieran vía impuestos a la sociedad

algunas veces son alabados esa sociedad se merece que hagamos todo lo que está en nuestras manos por acabar con la lacra del fraude por lo tanto esa es nuestra propuesta y creemos que es una respuesta a lo que pide la sociedad y al compromiso que tenemos con la sociedad de dejar
que la lucha contra el fraude va en serio y vamos a poner todos los medios en ello eskerrik asko eskerrik asko pinedo andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txanda

legebiltzarkideok egun on cuánto recaudan las haciendas vascas en la lucha contra el fraude imposible saberlo porque cada una contabiliza cosas diferentes cuántos inspectores fiscales hay en euskadi yo no lo sé

están menos guardados que la información sobre el fraude fiscal en euskadi hitz gogorrak

me estoy refiriendo a la comparecencia en la comisión de hacienda y presupuestos a raíz del informe que el gobierno vasco mandó realizar a tres catedráticos de la upv

ya que el propio gobierno vasco impuso para la realización del mismo métodos estándar en vez de un análisis impuesto a impuesto

tal y como lo hacen los países más avanzados y que sin duda hubiera sido más efectivo esto quiere decir que los modelos señalados en la convocatoria

dejan de medir una parte importante del fraude en particular el que se materializa mediante el enmascaramiento de rentas incluida la ingeniería fiscal la deslocalización de rentas y la ocultación de rentas en el exterior casi nada aun y todo este informe dibujó un panorama desolador para euskadi gracias al mismo

y dos mil catorce el fraude fiscal de la comunidad autónoma de euskadi se situó

y este resultado además no es fruto de la casualidad ya son varios estudios y estimaciones que sugieren que el fraude fiscal en la comunidad autónoma de euskadi

y dos mil catorce la pérdida de recaudación en euskadi ascendió

del total de los tres mil setecientos millónes de euros algo más

el cincuenta y cinco por ciento del total corresponden a impuestos gestionados y fiscalizados por administraciones vascas claro como de costumbre y para sacar pecho podemos mirar a los vecinos del sur pero esta vez ni así salimos muy bien parados

en el estado español solo se sitúa entre uno y dos puntos porcentuales por encima que el de euskadi sin embargo si miramos a los países con mayor control

por ejemplo sí podemos observar cómo realmente sí salimos mal parados ya que en estos países la economía sumergida un indicador

se sitúa entre el siete y el diez por ciento del pib desde elkarrekin podemos

ya que este conlleva a consecuencias muy negativas tanto para la economía como para la sociedad en general la consecuencia directa del mismo

es la menor recaudación por parte de las haciendas en eso creo que estamos todos y todas de acuerdo es decir en la pérdida de ingresos para poder lograr una mayor redistribución de la riqueza

el fraude fiscal afecta a la equidad y a la legitimidad del sector público para demandar de forma generalizada el pago de impuestos a aquellas personas que sí los están pagando

que no se esfuerza a la hora de exigir que paguen aquellos o aquellas personas que más tienen cuando son estas personas las que también más medios tienen para defraudar

para reclamar el pago a las personas que no defraudan el fraude fiscal ha incentivado a los gobiernos a realizar subidas de presión fiscal a las clases medias con el fin de conseguir la llamada estabilidad presupuestaria

los gobiernos en los últimos años en vez de invertir en la lucha contra el fraude fiscal para que paguen aquellas personas que tienen una mayor renta y mayores medios para defraudar han decidido que paguen más la mayor parte de la ciudadanía simple y llanamente

que justamente están cumpliendo con sus obligaciones para con toda la ciudadanía no podemos obviar además

diversos estudios ya demuestran que por cada euro invertido en la lucha contra el fraude fiscal diez euros son recaudados para las arcas públicas diez euros

diez euros que podrán ser utilizados probablemente en años posteriores para que los siguientes presupuestos no tengan una y otra vez el apellido sin holguras

a la inclusión social a la sanidad a la educación o a planes dirigidos para la creación de empleo de calidad la ciudadanía está harta

para pagar menos o para no pagar nada es necesario ponerle fin a esta práctica tan generalizada en ciertas esferas es necesario luchar y poner los medios suficientes para acabar de una vez con todas con el fraude fiscal y sin duda la mejor manera para atacar al fraude fiscal tal y como diversas personas expertas en la materia han manifestado más de una vez es mediante la creación de un observatorio fiscal

ya que la comisión de lucha contra el fraude compuesta por el gobierno y las tres diputaciones ha demostrado andar un camino que sin duda va a ser mucho más eficaz

de más medios es mucha

para empezar es necesario realizar un análisis desde una perspectiva impositiva y microeconómica un análisis que analice impuesto a impuesto qué métodos se utilizan para defraudar y quiénes son las personas que defraudan ya que las prácticas del fraude es la vía más importante mediante la cual las grandes empresas practican una competencia desleal e ilegítima frente a las empresas vascas que tributan en nuestro territorio

a las prácticas de elusión fiscal que también en euskadi

y que suponen el setenta y cinco por ciento del fraude fiscal asociado a los beneficios empresariales pero no solamente es imprescindible la creación de un observatorio contra el fraude fiscal

anteriormente sino también es necesario implementar las medidas efectivas para ejercer el control y la sanción del fraude medidas como las que se han a implementar con la comisión de lucha contra el fraude pero que es preciso y desarrollar en base a un trabajo especifico del observatorio independiente contra el fraude fiscal además los resultados de la citada comisión

muy mejorables con la participación también de más agentes sociales implicados en la actividad económica como pueden ser los sindicatos o las organizaciones sociales

en definitiva porque el sistema actual no está dando los resultados

y por ello creemos que es imprescindible la creación de un observatorio en euskadi un observatorio fiscal que sea independiente de los organismos públicos un observatorio fiscal que esté acompañado de una dotación presupuestaria

un observatorio fiscal cuyo trabajo pueda servir para la ampliación y el desarrollo de procesos de control y sanción en la lucha contra el fraude fiscal

de justicia en definitiva un observatorio contra el fraude fiscal que obligue a cumplir la ley a aquellas personas que una
y otra vez nos están robando a todos y a todas eskerrik asko eskerrik asko

muchas gracias señora presidenta en el primer párrafo de la exposición de motivos de bildu nos dicen

con suficiente recursos para responder a las prioridades existentes y en esta

no tenemos dinero suficiente para las prioridades pero se nos plantea vamos a crear un organismo que nos va a costar dinero no nos dicen cuánto no nos dicen cuánto pero que de entrada nos va a costar dinero la legislatura pasada

yo creo que de todos los grupos que estábamos en esta cámara se creó la comisión de lucha contra el fraude fiscal y que se suponía

a mejorar la lucha contra el fraude fiscal y de hecho todo el mundo

los resultados eran buenos que los resultados

ahora se nos propone crear otro organismo que nos cueste dinero que sea independiente que esto me lo tendrán que explicar alguno de ustedes esto de independiente que lo cree el gobierno vasco pero que sea independiente cómo nos lo

porque qué es eso de independiente pero aparte de todo eso en fin yo creo que más independientes que los señores funcionarios inspectores de hacienda que son los que se dedican a eso incluso cuando gobernaba bildu en la diputación de gipuzkoa y que todos en esta cámara

pues no entiendo que alguien nos plantee que hay alguien más independiente que esos funcionarios estos inspectores de hacienda que son los que trabajan

para mí son suficientemente independientes y eso que podría tener mis duda porque aquí en función de las inspecciones que ha tenido cada uno puede tener sus dudas de por qué a unos se les inspecciona y a otros no

qué nos plantean ustedes en la transacción crear este organismo que según bildu es crear más herramientas en la lucha contra el fraude yo no veo en qué mejora

puedo entender que ustedes nos digan como los servicios de inspección de las tres diputaciones son pocos hay que dotarlos de más medios pero como eso también se lo preguntamos aquí

verdad pues nadie ha planteado que hagan falta más medios qué nos proponen que este organismo independiente

trabajará para ampliar y desarrollar procesos de control y sanción en la lucha contra el fraude fiscal y entonces claro

que no tiene competencias va a trabajar en sanciones en la lucha contra el fraude yo leo trabajará para ampliar y desarrollar procesos de control y sanción en la lucha contra el fraude fiscal además señor bollaín su última frase

que además este organismo sirve el observatorio que obligue a cumplir la ley oiga vamos a ver que obligue a cumplir la ley en una democracia separación de poderes

esto de obligar a cumplir la ley obligar a cumplir la ley estamos todos obligados a cumplir la ley no necesitamos crear nada para que haya la obligación de cumplir la ley ahora sí hay sí hay organismos encargados específicamente de que esa ley se haga cumplir se haga cumplir y para eso está la inspección fiscal y para eso están los jueces en el caso de que haya además delito fiscal

cuantificar el fraude fiscal mire yo no voy a entrar en esto de cuantificación porque nunca he entendido que

el fraude fiscal es tanto y no vaya a la inspección fiscal a decir oiga que hay este fraude fiscal y aquí

en eso evaluar el cobro de las deudas evaluar la eficacia de la lucha contra el fraude fiscal oiga

los que tenemos que hacer eso somos nosotros son los parlamentos los que evalúan si están de acuerdo o no o si los ejecutivos lo hacen más o menos bien o no lo hacen tan bien y en este caso las juntas generales de los tres territorios pero cómo aquí un organismo no sé qué independiente va evaluar si las políticas están bien o no no no no eso lo haremos nosotros eso lo haremos nosotros

y las juntas generales respecto a las de las diputaciones proponer medidas destinadas a la lucha contra el fraude fiscal mire yo no he oído en aquel estudio porque yo estaba

se prohíbe el dinero en metálico y que se pague todo con tarjeta y ahí no se escapa nadie cuando a algunos se nos habla de algunos países donde hay poco fraude fiscal

caña así te cuesta ocho euros la gente va con tarjeta paga todo con tarjeta paga todo en los bares los taxis todo se paga con tarjeta claro fraude fiscal es poco entonces

por ejemplo eso es una medida pero yo en ese estudio además de que han desfilado por las juntas generales de bizkaia hace un mes y ya estuvieron aquí hace un año nadie vimos la necesidad de crear este organismo y nadie lo planteamos porque entre otras cosas estaba recién creada

fiscal proponer medidas destinadas a la lucha contra el fraude fiscal pero quién mejor las puede proponer que los propios inspectores que están en ello y que son los que nos tienen que decir hace falta más medios hace falta modificar esta norma que es lo que nosotros les hemos pedido siempre cada vez que han venido aquí

y yo les voy a decir una cosa a mí la palabra observatorio no me gusta porque yo creo que

pero también les diré que hay un observatorio del delito fiscal

formado por funcionarios de hacienda y la abogacía del estado

delitos fiscales para plantear qué normativas hay que cambiar para plantear cómo se actúa mejor contra los delitos fiscales pero son funcionarios

son funcionarios de la abogacía del estado y de la agencia

dar a conocer iniciativas y propuestas de diferentes agentes oiga cualquier agente que quiera proponer una medida de lucha contra el fraude fiscal lo puede hacer ya pero lo puede hacer en las juntas lo puede hacer aquí lo puede hacer

gastar dinero en crear un organismo para que vaya la gente a hacerle propuestas

ya estamos y no es ningún temor ni nerviosismo hacen falta más medios

pues a las inspecciones el señor bollain nos decía que no sabía cuántos inspectores fiscales había oiga ustedes tienen grupo en las tres juntas generales sí sí usted ha empezado diciendo que no sabía cuántos inspectores fiscales había

en los presupuestos de todas las administraciones viene el personal en cualquier caso creo que pueden preguntar en cada una de las tres diputaciones a ver cuántos hay y también técnicos y más gente claro pueden preguntar si tienen dudas de cuántos hay

nos ha planteado yo lo que le digo es que incrementar este gasto no aporta nada en la lucha contra el fraude

y en ese estudio que ustedes defienden y que ustedes nos plantean la gran propuesta que se hacía era que las diputaciones no han sido capaces de transmitir a la sociedad

y es complicado que las diputaciones trasladen eso cuando cada tres meses en este parlamento por ejemplo se está diciendo que es que no luchan o luchan poco contra el fraude fiscal

un organismo para transmitir que las diputaciones ya luchan contra el fraude fiscal y mientras tanto vamos a decir que no luchan para crear el organismo para que el organismo lo diga

a mí se me ocurren varios calificativos para plantear esta iniciativa y quienes lo plantean pero creo que ha quedado claro que no somos partidarios

egun on guztioi vamos a debatir hoy una propuesta que ha presentado eh bildu

que es la creación de un observatorio inicia a los proponentes para introducir la propuesta una reflexión que ya pudimos debatir hace dos plenos aquí sobre la utilidad de la fiscalidad como un instrumento para construir un proyecto de país

porque convenimos en aquel debate que la fiscalidad es una de las herramientas más importantes para lograr mayor igualdad

y justicia social una herramienta potente para construir una sociedad más justa en tanto que la fiscalidad sirve para dotar de recursos suficientes a las administraciones públicas para sustentar el mantenimiento de los servicios y de las prestaciones

el crecimiento y la creación de empleo en aquel debate coincidimos en ese fondo pero no fuimos capaces de consensuar una propuesta y así

a la importancia capital que tiene la lucha contra el fraude fiscal debate en el que los socialistas hemos estado desde el principio y del que seguiremos haciendo bandera no creo que necesitara recordárselo porque estoy segura de que todos ustedes han leído con mucha atención y detalle

y habrán comprobado que la lucha contra el fraude fiscal es uno de los puntos que expresamente queda recogido en este acuerdo porque a pesar de que en esta materia se han ido dando pasos y sería bueno que en esta tribuna todos cuando intervengan empiecen diciendo que se están dando pasos en lucha contra el fraude fiscal porque a nosotros también nos toca o nos corresponde convencer a los ciudadanos

ambos partidos coincidimos el partido socialista y el partido nacionalista en la necesidad de seguir avanzando

porque el fraude fiscal es un problema de país así lo han dicho también y no de unas u otras administraciones porque a todos nos afecta por ello es fundamental que la lucha contra el fraude fiscal tenga su base en una actuación coordinada entre todas las instituciones con planes

por este capítulo y establecer un catálogo de actuaciones en materia de prevención y lucha contra el fraude que ponga cerco a aquellos que haciendo gala a una insolidaridad manifiesta se quieren escapar sin pagar lo que les corresponde como les he comentado en los últimos años se han dado pasos importantes en lucha contra el fraude fiscal

y se creó ya lo han dicho por unanimidad de este parlamento la comisión de lucha contra el fraude fiscal en cuya composición trabajan las tres diputaciones forales los servicios de inspección

porque solo es posible dar la batalla a esta lacra del fraude fiscal desde la colaboración estrecha

esta comisión elabora desde el año dos mil catorce hay que recordarles que el estudio de la universidad de los catedráticos de la universidad finaliza en el año dos mil catorce toman sus datos hasta el dos mil catorce

y emisión de informes anuales integrados con los resultados obtenidos que se toman además como base para la realización del plan del siguiente ejercicio el trabajo se está realizando puede mejorarse claro que sí siempre se puede mejorar en lucha contra el fraude fiscal porque todavía estamos en unos parámetros

que es necesario desarrollar una metodología para evaluar anualmente la eficacia de las acciones del plan anual conjunto que desarrollan las haciendas forales porque no nos olvidemos que el plan solo lo pueden desarrollar las haciendas forales

modelos de análisis no desdeñamos los que existen tampoco lo hacían los catedráticos que alguno aquí en la tribuna parece que sí no lo hacían hablaban de que la literatura

otro existía y en concreto el que permite conocer por cada figura tributaria qué elementos del impuesto son los que se defraudan qué métodos utilizan y quiénes lo hacen pudiera ser conveniente que avanzáramos en esa línea

los instrumentos que tiene el eustat y que también nos lo dijeron los catedráticos pero parece que de aquellas cinco conclusiones solamente les interesa una

esas funciones que ustedes le meten al observatorio ya las tiene la comisión de lucha contra el fraude

ni creemos que sea una cuestión de nombre lo que tienen que realizarse son esas funciones la comisión de lucha contra el fraude y la recuerdo según el mandato de este parlamento tiene entre sus funciones

la evaluación de los resultados obtenidos con las medidas desarrolladas la valoración de la eficacia de las mismas la realización de propuestas de mejora en la lucha contra el fraude

y que posteriormente será publicado como pueden ver las funciones de ambos organismos

sino que creemos que puede ser mucho más eficiente que sea esta comisión la que desarrolle y proponga medidas para la cuantificación del fraude que es el apartado que exactamente

sus funciones de todas formas quisiera recordarles que el informe que hoy

proposición no de ley de eh bildu y que no es más que una aproximación a la cuantificación del fraude fiscal y de la economía sumergida que es uno de los propósitos que tiene

no tiene su origen en ningún observatorio sino en una enmienda a los presupuestos del ejercicio del dos mil quince que fue presentada por el partido socialista y que entonces fue minusvalorada por otros grupos

a la universidad la realización de un estudio sobre ello y hoy contamos

porque para esto sirve la negociación presupuestaria para poner en marcha medidas o acciones que avancen en la dirección que creemos correcta

aprovechando el tiempo que me resta en las que yo creo que desde los grupos políticos desde los políticos y como representantes públicos

la lucha contra el fraude fiscal también nos corresponde a nosotros y una parte importante de esa lucha contra el fraude fiscal es la concienciación de la ciudadanía de que aquel que no paga está siendo insolidario

por eso cuando ustedes solamente hablan de una parte de lo dicho por los catedráticos y no de la siguiente

si era el misterio de fátima saber cuál era el número de inspectores lo matizó

en el segundo turno de intervención y lo que vino a decir es que no era una información que no estuviera publicada que lo estaba que no estaba

conocía dónde podía buscar esos datos y que les había faltado tiempo que había habido voluntad pero que había faltado tiempo para poder terminar algunas otras conclusiones a las que a ellos les hubiera gustado llegar

bueno y es más decían también por qué o cuál era uno de los motivos por los cuales el fraude fiscal en el país vasco estaba en un veinte por ciento por debajo del que había a nivel del estado y por qué estábamos también en el promedio de la unión europea y yo lo he traído porque como les gusta hacer así con la mano y a mí me gusta traer le traigo el acta de la comparecencia del señor zubiri y le voy a leer textual

en la página siete párrafo segundo dice

las diputaciones forales también han hecho una tarea más efectiva en el control

hay un fraude que es un veinte por ciento inferior al del promedio de españa aunque también no deja de ser un elemento de preocupación lógicamente porque lo razonable sería poder llegar

cero aunque todos sabemos que eso es algo muy difícil pero por eso les digo que parte de ello nos corresponde a nosotros también nosotros tenemos que hacer pedagogía no podemos salir de aquí pensando que no se lucha contra el fraude fiscal no podemos pensar aquí que no se ha avanzado con la interconexión de datos con las nuevas obligaciones informativas con el cruce que se realiza a través
de los sistemas informáticos y las auditorías informáticas que se realizan en las diputaciones forales se puede hacer más sí pero se está haciendo mucho eskerrik asko castelo

que tenemos que dotarnos de herramientas para prevenir el fraude fiscal

zuk puntu bat hartu duzu eta zer den esaten duena el primer trabajo sobre el fraude fiscal en la comunidad autónoma de euskadi y en los territorios históricos viene

zer dio ere bai txostenak el segundo trabajo en mil novecientos noventa y uno por encargo de quién del órgano de coordinación tributaria de la comunidad autónoma de euskadi

egiten da eta egiten jarraituko dugu eta hobetzen jarraituko dugu esan duzu necesitamos herramientas porque tenemos que tener experiencias de otros países para traerlas aquí

en la lucha contra el fraude eta berdin beste lurraldeetan

martxan daukagunean erakunde bat no entendemos y sinceramente creemos que va radicalmente radicalmente en contra de los que eh bildu está planteando en otros ámbitos

un órgano creado la legislatura pasada en este mismo parlamento

y del gobierno vasco en el seno del órgano de coordinación tributaria y ustedes además están diciendo que debe sacarse fuera el desarrollo de algunas funciones que son competencia de las haciendas forales no entendemos

porque la limpieza de urduliz se saca a contratación

pero no tienen ningún problema para plantear una medida donde todos los datos fiscales van a salir fuera para que alguien los trate y saque conclusiones eskerrik asko

en las bancadas del gobierno mire una búsqueda rápida observatorios vascos observatorio vasco de la vivienda observatorio vasco de la cultura

observatorio vasco de la inmigración observatorio vasco de la economía social observatorio vasco de servicios sociales etcétera etcétera treinta segundos de búsqueda

pero el observatorio vasco sobre el fraude fiscal eso no señorías eso no porque esto es una barbaridad es básicamente es más la señora gorospe se permite el lujo porque se lo va a decir así

va en contra de los principios de eh bildu de eso nada señora gorospe de eso nada

tantas veces han alabado y yo he estado con ellos en muchas ocasiones con los técnicos

concretas porque son inspectores de hacienda y hacen las cuestiones respecto a lo que les corresponde como inspector de hacienda y lo que aquí estamos planteando es algo

estamos hablando de un observatorio sobre el fraude fiscal un observatorio sobre por dónde viene el fraude fiscal cómo se mide el fraude fiscal

cuestiones académicas que no las van hacer nunca los técnicos de las haciendas vascas

me viene a poner sobre la mesa que se hizo un estudio en el ochenta y tantos en el noventa y tantos sí

de los ochenta me paso a los noventa de los noventa me paso al dos mil doce

y es que no es que lo diga yo es que lo dicen los propios académicos

que se necesita tener un estudio continuado sobre el fraude fiscal para poder hacer una lucha realmente contundente contra el fraude fiscal porque lo que no se puede estar es al salto de la mata y estamos al salto de la mata una y otra vez

y la señora castelo me dice que bueno que las enmiendas sirven para eso que en la negociación presupuestaria que en

para avanzar en la consecución de medidas correctas mire señora castelo esta enmienda era no me acuerdo exactamente del dinero porque ahora mismo no me acuerdo pero era un alfiler rotondas polideportivos y subvenciones varias a grupos afines al partido socialista por lo tanto de verdad no me dé ejemplo de cómo se tienen que hacer las enmiendas a un presupuesto

en tono despectivo era lo más fácil redactar esta propuesta y no redactar el resto de eso nada

sobre todo y las hemos leído claro que sí pero creíamos que esta tenía

señora castelo no me haga así porque sí porque sí la tiene porque sí la tiene porque ustedes

que nos dé más información contra el fraude fiscal porque claro es mucho mejor estar en lo que estamos y otra vez lo técnico con lo político me recuerdan ustedes al diputado general el diputado de hacienda de gipuzkoa que dice que toda la política fiscal es una cuestión técnica

de un partido político entonces llevando la cartera de hacienda que pongan a un funcionario y acabamos mucho más fácil y todo esto al final es porque ustedes no quieren ser claros y no quieren

lo de que la evaluación tiene que estar en manos de los parlamentos únicamente mire

porque total para qué queremos organismos independientes pues nada sigamos haciendo

porque ya ha dicho que lo que no quiere es que estos presupuestos se vayan a la extrema izquierda

eh bildu y podemos claro es mucho mejor bajar impuestos que se lo lleven calentito los de siempre y que paguen los de siempre señor damborenea porque a eso es a lo que estamos y hoy estamos otra vez en lo mismo

de un triunvirato bueno pues será un triunvirato pero es a lo que ustedes nos están poniendo

hemos hecho diferentes propuestas en relación a asegurar unos ingresos dignos a las arcas públicas de este país y ustedes una y otra vez

eso sí cuando hay que traer las cuentas con llorar y decir que no hay lo que hay ahí con eso suficiente pues sigan ustedes así porque nosotros seguiremos en nuestro trabajo

medidas a favor de una política fiscal justa y no

señor damborenea nos decía usted que nos va a costar dinero esto bueno le he comentado yo antes también cómo diversos estudios

revierte diez euros para las arcas públicas hablaba de los resultados de la comisión que estamos todos

lo que pasa es que no todas las personas cumplen la ley no todas las personas cumplen la ley y eso se ve claramente en los datos de la comisión que no son suficientes y hay que

intensamente en ello podemos observar en los informes disponibles de la comisión que en dos mil catorce se recuperaron setecientos setenta millónes de euros

cantidades que van descendiendo además de un ejercicio a otro y aún

de euros anuales de fraude esto ya es una cuestión trasversal comentaban

que era independiente claro decían que había que luchar en el parlamento de un plumazo borramos a la sociedad civil a las organizaciones sindicales a las organizaciones sociales a las personas profesionales e investigadores en la materia eso es independiente un observatorio que tenga en cuenta la opinión de la sociedad civil

de las organizaciones sociales de las personas profesionales y de las personas investigadores en esta materia

yo también como la señora pinedo podría seguir leyendo observatorios como el observatorio vasco de la economía social

pero bueno creo que ahora mismo no viene al tema decía la señora castelo que era fácil redactarlo a lo mejor no lo sé lo que sí sé

llegar a un acuerdo entre elkarrekin podemos y euskal herria bildu para luchar más intensamente contra el fraude fiscal se ve que a otros partidos parece que no les interesa tanto

qué es lo que pasa que algo estamos haciendo mal porque

las preocupaciones prioritarias de la ciudadanía la primera era la economía y el empleo lógicamente con un nueve coma uno sobre diez

con un ocho coma sesenta y nueve sobre diez algo estamos haciendo mal si esa percepción tiene la ciudadanía de nosotros

que no sabemos el número de inspectores fiscales lo dijo en la comisión ignacio

lo que han dicho ustedes y lo que ha dicho la señora gorospe la información si no es accesible

imagina para la ciudadanía imagina para la ciudadanía porque la transparencia si no es fácilmente accesible no es transparencia

me gustaría decir que a ver si luchamos un poquito más si ponemos las bases reales independientes para luchar contra el fraude fiscal y que acabemos de una vez en euskadi de escuchar la frase llegar a rico me costó lo vuestro eskerrik asko

señor bollain no todas las personas cumplen la ley nos ha dicho si yo creyera que creando este

iba a ocurrir que todas las personas iban a cumplir la ley le aseguro que cambiaba el voto ahora mismo pero sabe lo que ocurre que no me lo creo que los que defraudan van a seguir defraudando con este observatorio bueno si alguien se da por aludido él sabrá yo ahí claro es que decir

la van a incumplir siempre creemos un observatorio o creemos el chiringuito que se quiera crear

a lo mejor sale de aquí algo bueno por qué no hacemos en este parlamento un estudio a ver cuántos sobran porque no nos aportan nada y nos cuestan dinero

por qué no hacemos eso vamos a plantear eso a ver cuántos observatorios organismos tenemos por ahí cuánto nos cuestan y cuál ha sido su utilidad real para los ciudadanos no estaría mal me cita el ararteko el ararteko claro que es independiente pero el ararteko se crea

para evitar los excesos del gobierno y usted me dice que el observatorio que nos proponen es más amplio que la inspección fiscal pues hasta donde yo he leído el título y las funciones son las mismas que la comisión contra el fraude fiscal los mismos

y ustedes nos proponen que por cierto no me han respondido cuando hablan de dotarlo económicamente de cuánto es y cuándo les he preguntado la independencia esta quiénes son y cómo se hace y a estas dos preguntas no me han respondido ustedes y

yo creo que hay que poner un poco de orden y organización en este parlamento porque extrema izquierda a lo mejor eran ayer pero yo tengo que recordar aquí que liberal soy yo

yo no soy el que está proponiendo privatizar la lucha contra el fraude fiscal yo no soy entonces un poco de orden

algunos pero desde luego los liberales nunca hemos planteado que servicios públicos que tienen que ser públicos y por funcionarios

ni que haga falta ningún organismo independiente fuera de la administración para hacer nada semejante y por lo tanto un poco de respeto a los liberales no planteamos estas cosas y oiga vuelvan ustedes a lo suyo pidan más inspectores fiscales

yo no sé si es cuestión del nombre o de las funciones

cuantificar el fraude fiscal esa ahora no está en la comisión de lucha contra el fraude ampliémoslo

esa sí está solo tienen que coger el boletín cuando se creó la comisión del fraude fiscal y ahí van ustedes relacionando el fosforito lo he ido subrayando vale evaluar el cobro de deudas también analizar experiencias lo hacen

dar a conocer iniciativas mira esa no pero cuando ustedes me dicen que en el tema de lucha contra el fraude fiscal también es importante tener en cuenta la aportación de asociaciones

sindicatos etcétera hay veces que los colectivos son importantes pero los más importantes los más

suelen ser aquellos funcionarios experimentados que llevan años trabajando y viendo cómo se intenta pasar sin pagar la factura yo creo

nos estamos haciendo igual trampa con respecto a la denominación

los tres catedráticos en su propuesta realizan no sé si va a lo que ustedes están proponiendo porque la señora gallastegui en un momento de esa comisión

nos dice en este país se podría hacer esto la universidad está para estas cosas o sea que lo único que pedimos es una confianza

podamos seguir investigando y mucho con mucha mucha frecuencia en cómo va evolucionando el fraude

que pueda seguir estudiando cómo evoluciona el fraude no piden para nada más

es más habla de que se haga un observatorio universitario páginas cuarenta y uno y cuarenta y dos

comprobarlo entonces realmente yo creo que el observatorio que ustedes piden es la comisión de lucha contra el fraude que ya pusimos en marcha si hay que cumplimentarlo en alguna función pongámonos

como lo de la reforma fiscal que a todos nos suena la música pero no somos capaces de ponerle

esta enmienda que presentó el partido socialista era un alfiler pues es un alfiler al que ahora se agarran ustedes

para poder hacer una proposición no de ley que parece ser que de otra forma no se les hubiera ocurrido porque la única propuesta por cierto también a rebufo del partido socialista que hace eh bildu en el año dos mil trece con respecto al fraude

de las bases de datos que por cierto también hemos avanzado en eso a nosotros no nos importa tenerles como compañeros de viaje en la cuestión de lucha contra el fraude y en el tema de la suficiencia de los ingresos de las administraciones públicas nos pueden tener al lado solamente tienen que quererse dejar y a veces les molesta mucho la compañía háganselo mirar de todas formas cuando yo quise decir que era fácil redactar la enmienda y no me había referido a la de podemos la de podemos no la he entendido sin más

manifestar aquí en tribuna porque no he llegado a entender qué quería decir usted cuando nos proponía

esta especie de gemelitud que tienen ustedes aquí y que nos vienen demostrando

y con ellos consiguen transaccionar y con los demás no ustedes también sabrán por qué porque a mí con este tema tan siquiera se han dirigido así es difícil que pueda acordar con ustedes si tan siquiera me llaman para saber mi opinión porque claro cuando usted me dice que hay que poner en marcha medidas efectivas

que tengan una dotación presupuestaria suficiente dije pues claro normal si ponemos una medida y tal y que además se pueda realizar por el gobierno vasco un proceso de control y sanción

no se ha aclarado usted con la arquitectura institucional y está confundiendo las competencias que ya le ha pasado en otras cuestiones pero mire usted aquí bases en la lucha contra el fraude fiscal las deberíamos de poner todos y lo digo la primera

digamos que la lucha contra el fraude fiscal ni un paso atrás todos hay camino por recorrer sí se lo reconozco lo estamos recorriendo sí y no me voy a poner pesada pero le voy a decir hay informes anuales en juntas generales solicítelos

tenemos la interconexión de datos el intercambio entre administraciones planes conjuntos e integrados

y que continuamos nuevos modelos y obligaciones informativas y nuevas restricciones para poder controlar a aquel que no quiere pagar la factura que le corresponda por tanto
no vamos a apoyar la propuesta que realizan eskerrik asko castelo andrea

qué es lo que entendéis por independiente señora pinedo qué es lo que entienden ustedes por independiente

qué entienden ustedes por independiente y no me ha contestado porque es que no saben qué están pidiendo no no saben y se ríen ustedes pero para que no se rían voy a hacer una cosa para que vean que no saben lo que piden porque ustedes están diciendo que quieren algo independiente alejado

el día ocho de febrero de dos mil diecisiete hace un mes en juntas generales de gipuzkoa

en relación con la propuesta del observatorio que ustedes hoy aquí están planteando y le voy a leer lo que el representante de eh bildu dijo

el hecho de que sea independiente hombre pues le da un valor añadido para nada pone en duda lo que pueda estar haciendo esta comisión contra el fraude

debería trabajar y trabaja y podría hacer otras cuestiones como ha dicho el señor diputado estamos hablando de técnicos de alto rango evidentemente expertos en la materia pero ahí queramos o no falta inputs en la lucha contra el fraude

es muy valiosa pero queramos o no queda coja queda coja porque el ámbito político tiene

se adoptan en el ámbito político y por otro lado agentes sociales que puede ser también el ámbito académico puede aportar

eso es lo que están pidiendo pues díganlo nosotros necesitaríamos saber argitu eta ez bikoiztu hori da eskatzen duguna eta argitzen duzuenean zer den

propuesta para poner en marcha una campaña informativa sobre el derecho de acceso a los servicios sociales y la traemos basándonos en dos premisas

ematen dion aitzindaritza bere gain hartzera y hay que hacerlo en nuestra opinión al menos informando a la ciudadanía porque el entramado

y es deseable caminar hacia un horizonte en el cual todas las personas que viven en euskadi sepan cuál es su servicio social de referencia y qué hacer si quieren ejercer su derecho a pesar de que sabemos que la ley contempla esta campaña que proponemos y que el plan estratégico también lo contempla

y lo entendemos por las siguientes razones porque la información es poder y seguro que en eso estamos todas de acuerdo

difícilmente conseguiremos que lo ejerzan o equipararemos el derecho de acceso a los servicios sociales a los de sanidad o educación porque también

pero todavía a día de hoy no hemos sido capaces de decirle a las personas cómo funciona este entramado y eso es algo que hay que solucionar en nuestra opinión de manera inmediata

porque la ley de servicios sociales reconoce en su artículo nueve sobre los derechos de la población titular el hecho de que puedan disponer de información suficiente veraz y fácilmente comprensible sobre las intervenciones y propuestas

así como acceder a su expediente y otras cosas que contempla la ley porque el entramado de funcionamiento de los servicios sociales es complejo pero si no hay una apuesta decidida por explicarlo de forma sencilla y directa los servicios sociales seguirán siendo el patito feo de los derechos reconocidos por este gobierno pero sobre todo

porque si aquí hay muchas profesionales que trabajan en el ámbito de los servicios sociales y están confusas en el devenir que está tomando todo esto

porque tampoco creemos que se pueda dejar al margen el estigma social que clásicamente han sufrido las personas que acceden a los servicios sociales si no hacemos un esfuerzo por cambiar esto

no vamos a conseguir que el sistema de servicios sociales lo sea nombrar el acceso el derecho de la ciudadanía es un paso pero como decía machado se hace camino al andar

instar a este gobierno a que de paso en ese sentido para que ni una sola persona quede fuera de algo que le corresponde

como los que corren porque también la ley establece mecanismos que ya deberían estar funcionando y que ya deberían ser conocidos

porque esta es una muestra de que el derecho a los servicios sociales no está llegando a todas las personas y nos toca hacer revisión de los hechos y darle una vuelta para mejorarlo toca también en nuestra opinión a fin de dar de contenido a la campaña porque ya sabemos que la ley reconoce

pero no lo único ni lo preferente sabemos que el plan estratégico de servicios sociales establece la necesidad de dar visibilidad hasta hoy escasa reconocido en el propio plan del sistema vasco de servicios sociales como un sistema

el plan de estratégico también reconoce el desconocimiento de la población que no la percibe ni como un sistema único ni tiene conocimiento de los servicios sociales de base como puerta de entrada al sistema

si esto es así y al margen de que haya cosas por mejorar en el desarrollo del sistema entendemos que hay que atender de forma preferente porque el propio plan estratégico una herramienta fundamental de trabajo da mucha importancia a la necesidad de realizar esta campaña informativa pero si no ponemos plazos a las cosas pueden terminar haciéndose de una forma precipitada poco consensuada o a la que demos poca importancia entendemos que seis meses es tiempo más que suficiente para

recordemos que la ley se aprobó en el año dos mil ocho esto está agendado para dos mil diecisiete pero el derecho está en marcha desde diciembre en fin

creo que el consenso a la hora de aprobar esta iniciativa es una muestra

de lo que la propia normativa reconoce o llevando adelante lo que la propia normativa reconoce pero sobre todo poner en un primer lugar

y es la accesibilidad de esa información a la que pretendemos acercar a la ciudadanía

central apuntamos a poner en marcha medidas de lectura fácil orientamos a que la información sea un bien que todas las personas podamos compartir y manejar

creo que con todo esto explicamos perfectamente la necesidad de poner en marcha esta iniciativa y de hacerlo con celeridad y con buenas intenciones así que solo voy a dedicar un minuto más a agradecer a los grupos firmantes y a los que van a apoyar con su voto

entiendo que para todas desde elkarrekin podemos como ya hemos dicho en otras ocasiones mano tendida para construir y mejorar en este sentido sí que

el interés de que el contenido de la campaña pueda ser compartido también antes de que se ponga en marcha creo que todas tenemos para aportar

debatimos en este punto quinto una proposición de podemos referente a la campaña informativa sobre el derecho subjetivo de acceso a los

servicios sociales y yo creo que evidentemente

hemos llegado a una enmienda transaccional todos los grupos hemos conseguido en este punto por lo menos hoy un consenso de todos los grupos y creo que además todos estamos de acuerdo todos los grupos políticos de la cámara en la necesidad de llevar a cabo esa campaña informativa el derecho a los servicios sociales está regulado en la ley doce barra dos mil ocho de cinco de diciembre además de regular y ordenar el sistema vasco de servicios sociales de carácter universal

y dentro del mismo establece ya el derecho subjetivo de acceso a los servicios sociales a todas las personas titulares del derecho que cumplan con los requisitos de acceso a los mismos y como bien saben señorías el pasado veintiséis de diciembre entró ya en vigor el decreto de cartera de servicios sociales que también hace referencia como no podría ser menos a ese derecho subjetivo de la ciudadanía al acceso a las prestaciones y servicios del sistema vasco de servicios sociales

el ciudadano tiene derecho a acceder y a exigir dichos servicios

fijados en ese decreto de cartera de prestaciones y servicios de sistema vasco de servicios sociales y cuando se considere idónea la prestación de este servicio para responder a las necesidades de la persona y por otro que las instituciones competentes tienen que garantizar esos servicios en los términos que se han venido prestando se trata de un derecho adquirido muy recientemente

de acceso a estos servicios sociales con carácter subjetivo por lo que puede haber una desinformación de la ciudadanía debido al poco tiempo transcurrido desde la adquisición de este derecho por eso mi grupo parlamentario los socialistas vascos consideramos que para que

con información de alcance de los mismos de una forma clara y manejable por todos

la necesidad de poner en marcha esta campaña informativa en breve porque como bien ha dicho la señora guanche si no conoces tus derechos es difícil que los puedas ejercer por eso hemos firmado la propuesta transaccional con todos los grupos parlamentarios de la cámara

y la desinformación existente entre la ciudadanía vasca el parlamento vasco insta al gobierno vasco a desarrollar una campaña comunicativa en un plazo de seis meses que busque dar a conocer este derecho de acceso al sistema

contenidos las formas de ejercer del derecho etcétera

de prestigiar y potenciar el acceso al derecho subjetivo y en segundo lugar

se utilicen elementos que garanticen la accesibilidad a la información y en concreto utilice la lectura fácil como una herramienta de trabajo que garantice una adecuada transmisión de contenidos en el pleno del quince febrero recientemente tuvimos ya el debate sobre la necesidad de contar con instrumentos de lectura fácil y ya señalábamos en el mismo que un treinta por ciento de la población tiene dificultades lectoras incluyendo personas con discapacidad intelectual

o personas recién llegadas y el acceso a la lectura es una necesidad social y un derecho reconocido

por ello creíamos que en esta iniciativa era conveniente y era bueno también y era muy positivo hacer esa referencia también a la necesidad no solamente de tener esa información sino que además esa información se realice

para poder llegar a toda la ciudadanía otra cuestión a tener en cuenta y que se señala dentro del informe del ararteko sobre la situación de los servicios sociales municipales en la comunidad autónoma de euskadi y elaborado en el dos mil dieciséis y que

ayer mismo el ocho de marzo destacaba dentro de sus conclusiones que existe una carencia de información suficiente disponible

ya que hay un desfase de dos años en la información recibida

pueden derivarse de la falta de registros indicadores homogéneos relativos a la actividad de los servicios sociales de base el sistema

ha de ser mejorado y aunque estemos hablando de otra información yo creo que también sería conveniente trabajar en una homogeneización de la misma para facilitar el acceso a la misma a los ciudadanos es importante desarrollar

quiero agradecer para ir concluyendo

clara una necesidad clara de información cuanto más conozcan los ciudadanos este derecho subjetivo al que han tenido recientemente acceso

más facilidades tendrán para poder ejercer todos sus derechos y para poder ejercer ese derecho subjetivo

pedimos al gobierno la puesta en marcha de una campaña comunicativa sobre el derecho subjetivo de acceso a los servicios sociales y que dicha campaña

tras la entrada en vigor de la universalización de la garantía de acceso a los servicios y prestaciones incluido en el catálogo

queda totalmente consolidado el derecho subjetivo de acceso a los servicios sociales y por eso creemos importante que la ciudadanía tenga conocimiento de los derechos y

la necesidad de poner en marcha una campaña de comunicación en este sentido en concreto la iniciativa

y el gobierno vasco tiene claro este compromiso hitzetatik ekintzetara pasatzeko momentua dela askotan esaten zaio jaurlaritzari eta esparru honetan

jaurlaritzaren konpromisoa argi erakusten duena por lo tanto nos

en la importancia de dar a conocer los derechos y obligaciones que supone el derecho subjetivo de acceso a los servicios sociales

serán capaces de acordar en el órgano interinstitucional de los servicios sociales la campaña publicitaria necesaria para dar a conocer el derecho subjetivo de acceso

y que las personas que cumplan los requisitos de acceso para obtener dichos servicios sociales tengan conocimiento amplio y claro de los derechos y obligaciones

a las citadas ayudas no se quede sin las mismas por falta de conocimiento mila esker eskerrik asko arregi andrea

se han hecho muchas referencias a esta cuestión y en concreto a lo que

estratégico de servicios sociales en torno a esta cuestión y señora guanche

va a salir por unanimidad uste dugu komenigarria dela

como decía la previsión de desarrollar una campaña

sociales y el acceso a los servicios sociales está prevista en el propio plan estratégico de servicios sociales en el propio informe del ararteko se habla también de la carencia es importante en relación con la información y disponibilidad sobre los servicios sociales municipales yo sí que quiero hacer referencia obviamente el tema de los servicios sociales hoy

el informe del ararteko nos ha dejado muchas carencias en el sistema vasco de servicios sociales

ausencia de un marco organizativo común que tiene que ver con que no se han cumplido las expectativas

a los diferentes servicios accesos desiguales todo lo que tiene que ver con la administración y sobre todo en los servicios sociales que se presta por parte de los ayuntamientos que como son la administración más cercana pero muchas veces no tienen los recursos

en definitiva de acuerdo con la iniciativa planteada y por lo tanto votaremos a favor besterik gabe eskerrik asko

bat zetorren eh bilduk defendatzen zuen posizioarekin el debate no es nuevo como señalaba ya tuvimos ocasión de debatir sobre esta cuestión la pasada legislatura se llegó a un acuerdo

partido nacionalista vasco partido popular y upyd que nosotros es el que hemos tratado de reeditar en la enmienda presentada en la iniciativa original de eh bildu la pasada legislatura

hubo otro acuerdo una enmienda de transacción entre eh bildu y el partido socialista que no salió porque obviamente la que salió aprobada en esta cámara fue la otra enmienda transacción

egon direla y ha habido avances desde el debate que tuvimos el pasado veinticinco de febrero del dos mil dieciséis en relación a esta

porque se ha avanzado en la equiparación de los permisos de nacimiento adopción y acogimiento entre los progenitores sí que es cierto que todavía queda

resaltar en esta primera intervención es ese avance porque desde el uno de enero del dos mil diecisiete está en marcha el permiso de paternidad de cuatro semanas

y también en la ley orgánica nueve barra dos mil nueve de ampliación del permiso de maternidad además quiero recordar que ya lo dije en el anterior debate que

a raíz de una propuesta concreta del partido popular por lo tanto yo quiero resaltar que ha habido un avance indudablemente

que vamos a participar en este debate nos gustaría que se avanzara más por eso nosotros presentamos una enmienda de transacción en la línea de lo que ya acordamos en la legislatura anterior es decir que se siga avanzando de forma gradual

gradual en esa equiparación y teniendo en cuenta las disponibilidades presupuestarias

desde el grupo popular creemos y además es la segunda vez hoy también que debatimos sobre temas de conciliación

en el ámbito de la competencia que tiene el gobierno vasco un impulso decidido ante los incumplimientos

real y por eso pedíamos incrementar en la primera iniciativa que hemos debatido esta mañana en relación a estas cuestiones de las ayudas por nacimiento y las ayudas

a las cuantías y al final hemos posibilitado que salga un acuerdo que como digo era para nosotros insuficiente pero esperemos

del gobierno adquiridos en esta legislatura y esperemos que sirva para que lo cumpla aunque nosotros desde luego sí que tengo que decir que en esa materia concreta

esta mañana otro de los ámbitos de actuación es el tema de avanzar en la conciliación y el tema de equiparación la forma de equiparar gradualmente los

pero también quiero decir que hay un marco a nivel del estado

recordar como puede ser el plan integral de apoyo a las familias que además fue impulsado y elaborado

también se han impulsado medidas que han facilitado la conciliación a los trabajadores autónomos bonificaciones a los trabajadores por cuenta propia cuando están en situación de descanso se ha reconocido por primera vez la maternidad en el sistema de pensiones hoy todos hemos tenido oportunidad de leer

vascas reciben un complemento de maternidad en su pensión y eso ha posibilitado que se incremente su pensión en un seis coma treinta y nueve

de media yo creo que eso es una forma y esas son las formas en este caso de reconocer la contribución de las mujeres trabajadoras en la

rural tengo también aquí que recordar los compromisos del gobierno actual en relación a impulsar un pacto para la conciliación y racionalización de horarios y un plan especial de igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito laboral y contra la discriminación salarial por eso a nosotros también nos gustaría que en línea con las actuaciones en materia de conciliación

por el gobierno de españa y con esa noticia se ve claro que son medidas que tienen un efecto

que reciben ese complemento en las pensiones por haber sido

en todas estas cuestiones y por eso en nuestra enmienda también instábamos a que el gobierno vasco presentara en un plazo de cuatro meses un paquete de medidas

facilitar la conciliación y sobre todo cuando hablamos de conciliación hablamos de conciliación con los menores y con las personas dependientes hemos estado cerca de un acuerdo aquí sí señora sánchez estuvimos hablando en este tema sí estuvimos hablando y además hasta

espero que una próxima vez sí sea posible y que desde luego nos fijemos más en los puntos de unión que en las desavenencias que yo creo que en este tema

nos hemos fijado más en los puntos de fricción en las desavenencias que en los puntos de unión eta

de nuevo en este punto vamos a hablar de conciliación y de igualdad igualdad en la corresponsabilidad y en la equiparación de los permisos de nacimiento adopción y acogida de niños y niñas en nuestra sociedad sigue siendo la mujer la que mayoritariamente se hace cargo del cuidado

mayores eso es una realidad que hay que cambiar si queremos conseguir alguna vez una igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres y avanzar en la corresponsabilidad dentro

y eso genera que las mujeres tengan la doble carga una doble carga de trabajo que los hombres con independencia del tipo

por esta situación no solo es una cuestión cultural perpetuada en el tiempo la mujer sigue sufriendo un trato diferenciado y discriminatorio

sigue sufriendo mayor precariedad laboral contratadas en mayor medida que los hombres a través de contratos temporales y a tiempo parcial

con cambios de horarios más sencillos todo ello dificulta mucho más a las mujeres poder conciliar su vida profesional y familiar y al percibir salarios más bajos que el hombre

que sea la mujer la que concilie dado que aporta menos ingresos a la unidad familiar es por ello por lo que para conseguir una verdadera igualdad no solamente

hacer muchas más acciones fundamentalmente también en el ámbito laboral hay cuestiones que no podemos modificar aquí y que le corresponden al gobierno de españa pero hay otras medidas que sí se pueden tomar por el gobierno vasco el aumento de los permisos de paternidad o mejor llamados de permisos de nacimiento adopción acogida de niños o niñas es uno de ellos

donde estos permisos pueden ser de igual duración para mujeres y hombres y eso

se involucren mucho más en la corresponsabilidad y por otro lado que no se castigue

porque de la misma forma el hombre o la mujer podrán hacer uso de esos permisos hay muchas medidas que pueden ayudar a conseguirlo

y que puede suponer un paso adelante que los socialistas iniciamos en la administración vasca

privada también se puede trasladar al ámbito del diálogo social fomentando

o como también planteamos desde el partido socialista establecer créditos de horas para atención a familias por igual para hombres y mujeres sin que esto afecte sus salarios

hoy en día su reconocimiento legal en todos los ámbitos en igualdad ha sido una conquista social

pero que todavía no ha tenido un reflejo en el ámbito de la conciliación ni en el nombre dado a los permisos de nacimiento adopción y acogida apostamos con claridad por que los hombres se incorporen en mayor medida al trabajo y cuidado doméstico y que participen plenamente en los cuidados de la familia tanto de los hijos de las hijas como familiares enfermos discapacidad señora etxebarrieta usted ha traído esta iniciativa reproduciendo una muy similar a la que se había planteado en la anterior legislatura y usted ha venido a crear

una polémica o a abrir una cierta grieta entre el partido nacionalista y el partido socialista

que este acuerdo literal al que se llegó en aquel momento la situación de entonces no es la misma que la que existe ahora mismo se han hecho cosas desde entonces se ha avanzado como ha dicho la señora garrido

legislativamente unas nuevas situaciones que en aquel momento no existían además se ha firmado un acuerdo de gobernabilidad entre el partido nacionalista vasco y el partido socialista en la que se da también una especial importancia a la estrategia seguida en el ámbito

y en este acuerdo también como he indicado

en mi anterior intervención en el punto tercero se incluyen una serie

como mejoras en el sistema de ayudas económicas incentivos fiscales medidas más efectivas en el campo de corresponsabilidad y la conciliación también el promover en la negociación colectiva medidas de conciliación laboral y familiar para fomentar una mayor

flexibilidad por eso yo siento que hoy no hayamos podido

que pueda salir en este punto aprobado algo y por tanto nosotros votaremos

que presentamos el partido nacionalista vasco y el partido socialista porque creo que recogía puntos que pueden mejorar aquí en nuestro ámbito en el ámbito de las acciones que puede llevar a cabo el gobierno vasco así como

a realizar en su ámbito otras y en esa enmienda a la totalidad se señalaba que el parlamento vasco insta al gobierno de españa a tramitar de forma inmediata una reforma integral del sistema de permisos y prestaciones de paternidad y maternidad para el cuidado y atención a las personas menores

que establezca un permiso de igual duración para cada progenitor e intransferible con una prestación máxima en su base reguladora y con igual

en su puesto de trabajo durante el ejercicio de los derechos de maternidad y paternidad que prevea un calendario de implantación de las medidas a adoptar así como su coste económico que la citada reforma utilice una denominación del permiso

y del mismo modo el parlamento insta al gobierno vasco a realizar el estudio de impacto económico de la equiparación de los permisos de parentalidad previstos en el primero plan de igualdad de mujeres

y sus organismos autónomos para que sean de igual duración e intransferibles y finalmente el parlamento vasco insta al gobierno vasco a que se remita

que contemple medidas para la conciliación de la vida personal familiar y laboral y que adecue la denominación de los permisos y licencias a las nuevas realidades familiares utilizando un lenguaje no discriminatorio creo que con esta enmienda se daban pasos avanzando más que

dentro de esta cámara y por tanto

firmarlo creíamos que podía ser posible firmarlos con el partido popular no ha sido tampoco posible en este punto sexto y por tanto pues nosotros vamos hacer lo mismo vamos a apoyar nuestra enmienda

totalidad y le insto al partido popular a que se lo piense y en vez de votar en contra vote a favor de nuestra enmienda a la totalidad para que así salga algo que permita avanzar en este

modu oso batean por otro lado nuestro grupo tiene claro que en cuanto a las medidas a adoptar en la equiparación de permisos ya sean por nacimiento adopción o acogimiento

estas deben ser las propuestas analizadas debatidas y consensuadas en el seno de la mesa de la negociación colectiva ese es el procedimiento y concierne al ejecutivo que gobierne en ese momento y a los diferentes sindicatos

quien tenga que proponer o establecer qué medidas se adoptarán en el seno de esa negociación y en este caso las medidas relacionadas con los permisos

ya han sido consensuadas y recogidas dentro del primer plan para la igualdad de mujeres y hombres de la administración general y sus organismos autónomos

a las medidas que de esta negociación deriven y que se recojan y encaucen este plan como decía fue publicado el diecinueve de octubre de dos mil dieciséis

para materializarlo se encuentra en el momento proceso clave de desarrollar la estrategia diseñada para la implementación del plan y más específicamente en el hito de constituir una comisión permanente de igualdad

y se establecerán las actuaciones a realizar durante el año dos mil diecisiete priorizando aquellas que la comisión considere más oportunas es por ello que entendemos fundamental realizar un estudio de impacto económico de la equiparación de los permisos en base a lo establecido en el citado plan

esto en lo que respecta a nuestras competencias en relación con la función pública hirugarrenik eta azken argudio bezala enplegu publikoaren

en su día cuando el grupo parlamentario eh bildu presentó esta iniciativa parlamentaria de la mano de la señora etxebarrieta no la enmendamos al entender que esta era una buena iniciativa

los argumentos escuchados hoy aquí seguimos pensando lo mismo los cuidados ese trabajo no reconocido como tal

no productivo y en consecuencia no suma en el cálculo del producto interior bruto de un país que solo incluye las actividades a las que

monetario un trabajo cuyo objetivo directo es la satisfacción de necesidades

se caracteriza por la realización de múltiples tareas al mismo tiempo por una componente de gestión constante de tiempos y espacios

es un trabajo donde la diferenciación entre tiempo de vida y tiempo de trabajo es sumamente dificultosa más aun cuando se combina con diferentes formas de trabajo remunerado en qué lugar situamos los cuidados en nuestro sociedad centro y motor de la vida y todo el sistema socioeconómico y cuando todo el sistema socioeconómico depende de él

parlamentaria los cuidados cumplen un papel estratégico ya que todas las persona los necesitamos en algún momento de nuestra vida para poder existir

según nuestra escasa o avanzada edad o según nuestro estado de salud por tanto el ideal de autosuficiencia es irreal ya que todas y todos somos

y las necesidades de la devaloración del capital es obvio que el sistema actual prioriza la segunda lógica con lo que resulta imposible responder simultáneamente a ambas y de ahí que surjan los problemas de conciliación porque minoritariamente los trabajos de cuidado

privado e históricamente han recaído y siguen recayendo en nosotras las mujeres con ello se invisibiliza dicha labor y al mismo tiempo se evita darle el valor económico que tienen las políticas de conciliación desarrolladas hasta el momentos están resultando una trampa para las mujeres

y vida personal ha terminado siendo un instrumento al que mayoritariamente se acogen las mujeres

que todas podamos ver también en el informe de impacto de género en presupuestos son contundentes sigue recayendo sobre las mujeres la responsabilidad principal

las mujeres no acceden en igualdad de oportunidades al mercado laboral es una vulneración de sus derechos y un despilfarro del capital productivo de las mujeres por ejemplo académicamente presentamos mayores niveles de cualificación y mejor rendimiento

la sobrecarga de cuidados en numerosas ocasiones les impide nos impide mantener la inserción laboral hacer carrera profesional y llegar a los puestos de toma de decisiones a nivel mundial la oit informa que las mujeres con hijos cobran cinco por ciento menos que las que no las posibilidades de convertirse en una trabajadora pobre según oxfam es

en euskadi la brecha de género en la tasa de ocupación se incrementa a medida que se va teniendo más descendencia cuando no se tienen hijos o hijas la brecha es del siete coma dos por ciento asciende hasta el quince por ciento cuando se tienen dos o más hijas es necesario es imprescindible considerar y contar con estos datos a la hora de diseñar las políticas de desarrollo económico empleo o trabajo pero no solo están comprometidas la inserción o la calidad del empleo al que acceden las mujeres

para la participación social o política el autocuidado de la salud el acceso a formación a propuestas culturales

los datos demuestran que todavía hoy se trata a las mujeres como las principales responsables del cuidado y por ende parece ser un problema exclusivamente de ellas exclusivamente de nosotras dentro de esa lógica a ellas a nosotras y no a los hombres se les hace responsable se nos hace responsables

a ellos no se les exigen cambios para compatibilizar trabajo y vida familiar creemos imprescindible superar este discurso y buscar soluciones reales

visibilizando el trabajo de cuidados y necesario para la sostenibilidad de la vida es necesario generar una responsabilidad social basada en la sostenibilidad de la vida

es urgente poner en valor los trabajos que hacen posible el mantenimiento de la vida y redistribuir las responsabilidades de cuidados

se vean de manera pública y no individualizada y privada es por tanto hora de superar el término conciliación y de hablar y poner en marcha

estemos en igualdad de condiciones tanto en el ámbito privado como en el público

con hijos e hijas hay que visibilizar y respaldar con medidas concretas

entre otras muchas que están brindando además bienestar a las personas que necesitan cuidado por eso

nacimiento adopción o acogida que se proponen en esta iniciativa propuesta por el grupo eh bildu

no es ni inclusivo ni justo que en familias compuestas por dos mujeres una de ellas hoy por hoy todavía siga teniendo que cogerse el permiso por paternidad también subrayamos y destacamos de esta iniciativa que los permisos sean intransferibles

no lo son las vacaciones ni la jubilación ni el fin de semana ni la prestación por desempleo por lo tanto tampoco deben serlo los permisos por adopción o acogida y aprovechamos para recordar que hay un número elevado de mujeres en familias monoparentales con hijos e hijas a cargo que pasan por numerosas dificultades

era contundente en este sentido según datos de dos mil catorce los niños y niñas en arreglos familiares de pareja heterosexual en situación de pobreza real eran un nueve por ciento frente al veintiséis de los que viven en familias monoparentales

estaban en situación de ausencia de bienestar frente a un cuarenta y siete en el caso de familias monoparentales estas gran olvidadas

a repensar las políticas para apoyar a las familias que no cumplen con el estereotipo

desde elkarrekin podemos creemos que esta iniciativa parlamentaria supone un paso más en el camino hacia la corresponsabilidad ahora bien queda mucho por hacer para superar las medidas

de las mujeres como el colectivo problemático siendo el principal objetivo de las sanciones y también en la idea de que las mujeres son madres y trabajadoras que deben ser ayudadas para que puedan conciliar trabajo y vida familiar planteamientos que nos parecen absolutamente erróneos y extemporáneos la corresponsabilidad de mujeres

y estado debe ser el faro porque todas las personas tenemos derecho a ser cuidadas y porque todas las personas tenemos

este debe ser el horizonte de todas las iniciativas y medidas que impulsemos en este parlamento es por ello que vamos a votar a favor de la iniciativa propuesta por el grupo parlamentario

eskerrik asko no tenía intención de salir pero

la señora sánchez decirle que no vengo a crear ninguna grieta entre el partido socialista y el jeltzale para nada vengo a trabajar por la mejora de las condiciones de los permisos y por conseguir la igualdad de derechos y responsabilidades

ve que esto es un problema o que pueda causar problemas

entre ustedes pero a mí no me venga a poner responsabilidades que no tengo yo venía a proponer

y para nada con ese objetivo y encima mi interpelación o la intervención que he hecho antes no iba para nada en ese sentido pero bueno me he sentido interpelada por lo que ha dicho y quería responderle a eso bai azpimarratu nahi genuen ere bai

en un tono un poco más amable y volver a reiterar mi agradecimiento al trabajo que hemos hecho al trabajo que seguiremos haciendo y sobre todo

a las familias diversas a las asociaciones como que nos demuestran que hay ganas que hay necesidades que hay otras maneras de hacer y que

y que por ellas seguiremos eskerrik asko eskerrik asko etxebarrieta

bertatik presidenta brevemente desde el escaño
no iba a intervenir pero como ha hecho referencia

a mí pues simplemente indicarle que vamos que no hay ningún problema desde luego en el acuerdo de gobierno que por esta iniciativa por supuesto que no pero lo que sí le estaba indicando con mi primera intervención es que

nosotros defendimos una postura en la legislatura anterior y yo lo que le he explicado es que desde la legislatura anterior a aquí desde que se trató este tema a aquí han ocurrido cosas se han aprobado a nivel legislativo una serie de mejoras desde entonces que cambiaban un poco la situación y también se ha firmado un acuerdo de gobierno entre partido nacionalista vasco y el partido socialista donde se pone en valor

una serie de mejoras que ya he hecho referencia a las mismas y que no voy a volver a repetir y que son muy claras y que van en esa línea de lo que entonces también nosotros defendimos con lo cual

las ganas de mejorar se ha mejorado desde entonces y por tanto por supuesto nosotros defenderemos nuestra enmienda a la totalidad la enmienda firmada por el partido nacionalista vasco
y el partido socialista porque sirve también para avanzar más en esa línea nada más y muchas gracias eskerrik asko sánchez andrea euzko abertzaleak

lehendakari consejera consejero señoras y señores buenos días bien yo voy a ser muy breve

en la legislatura pasada los grupos identificamos muchas necesidades de mejora del reglamento las pusimos sobre la mesa pero no se

en condiciones ahora debe de procederse de otra manera con más método o mejor método con determinación fundamentalmente

muchas cuestiones que afectan a diferentes extremos de la regulación reglamentaria

de las iniciativas de los procedimientos a participación en ponencias a control presupuestario a cuestiones que tienen que ver con el procedimiento legislativo a tiempos de las comparecencias a mociones a convocatorias etcétera las necesidades son amplias

en este momento desde luego desde el punto de vista del método del rigor

esto es una reforma necesaria va más allá y eso hay que considerarlo así una voluntad política

reforma técnica va más allá no en el reglamento del parlamento vasco que tener bien claro qué se canaliza se canaliza en el reglamento la voluntad política de la ciudadanía en lo que se refiere de los parlamentarios a nuestra función de control o de impulso al trabajo de los parlamentarios y de los grupos parlamentarios el reglamento de un parlamento el reglamento en este caso el nuestro es un instrumento muy importante es una estrategia muy importante es una herramienta muy importante

popular en el trabajo de los parlamentarios nosotros entendemos que hemos cumplido el objetivo con la presentación de la iniciativa y con la firma de la transacción hemos cumplido el objetivo de llegar a un acuerdo de trabajo de identificar

de análisis y de reforma y poner en marcha la maquinaria la maquinaria de ese análisis la maquinaria de esa reforma que parece ser y que en otras ocasiones ha podido dar la sensación de ser muy compleja de ser muy pesada y de no funcionar bien engrasada no es necesario revisar

del impulso parlamentario hay que tener en cuenta otras cuestiones la agilidad en los procedimientos la agilidad en el trabajo parlamentario superar algunas veces encorsetamientos reglamentarios de procedimientos

casi todos los días en nuestra práctica parlamentaria y el desarrollo

de comunicación de información de participación las posibilidades del trabajo de los parlamentarios y parlamentarias en esta cámara no era necesario asimismo

identificamos así concretar y concertar un plazo ese plazo va a ser inmediatamente después a este debate haremos la constitución

haremos el trabajo vuelvo a decir con ese método con ese rigor en relación con la modificación reglamentaria

legislatura identificamos necesidades y las detectamos los grupos parlamentarios pero también se detectaron y también se identificaron

y eso efectivamente es un factor de análisis también importante el informe de los servicios de la cámara hablaba de muchas cuestiones en relación con las necesidades

de la mesa de las declaraciones institucionales del plazo para la convocatoria de comisiones de la convocatoria automática de las comisiones de diversidad de plazos para las convocatorias

de tramitación en comisión de ponencias creadas en el pleno

y presupuestos de la cámara de publicidad de las comisiones de investigación de conclusiones de la comisión de estudio de comisión de peticiones de disposiciones generales de funcionamiento de sesiones extraordinarias y calendario de actividades de voto delegado

de ampliación y reducción de prórrogas de tramitaciones urgentes de plazo de gracia de contestaciones del gobierno de comparecencias en el procedimiento legislativo de enmiendas transaccionales en pleno etcétera etcétera de procedimiento de lectura única de designación del lehendakari

proponente en las proposiciones no de ley de votaciones de acumulaciones de plazos de presentación de mociones

e interpelaciones de debates monográficos son muchas cuestiones sobre la mesa son muchas cuestiones que bien podemos analizar y yo lo que tengo que

en los próximos meses y así hemos llegado a un acuerdo en relación con que el pleno del parlamento vasco insta a que en el plazo de un mes desde la aprobación de esta iniciativa y teniendo en cuenta los nuevos retos en relación con la información transparencia y participación de la ciudadanía se proceda a la constitución en el seno de la comisión de reglamento y gobierno de la ponencia prevista en la disposición adicional segunda del reglamento de la cámara y por otro lado que los trabajos a desarrollar esto es importante por la ponencia se iniciará a la mayor brevedad posible

según lo establecido en el reglamento de esta cámara antes de finalizar este año antes de finalizar el año dos mil diecisiete ahora lo que tenemos que hacer señorías es trabajar muchas gracias

ha dicho el señor barrio ahí estamos todos de acuerdo si bien es cierto que nuestro grupo

sí que es cierto que nos extrañaba que en las enmiendas realizadas por cualquiera de los grupos que ya llevan aquí unos años no se mencionaba en ninguna de ellas qué necesidades había reales de modificación del reglamento en la lectura que se hizo en dos mil once había comentarios como que a sabiendas de dos o tres meses habría que modificar el nuevo reglamento

terminaba su intervención señalando al menos dos de los aspectos en los que al parecer no había habido acuerdo la creación de una oficina de control presupuestario

todos nos conformamos con lo que tenemos es decir fue un cierre a medias en elkarrekin podemos coincidimos con una intervención de la pasada legislatura del señor iturrate que precisaba que las leyes deben ser dinámicas

un marco de juego que para todos los grupos parlamentarios debe ser claro y estable y no sometido al albur de los juegos de mayorías y minorías de cada momento

lo importante no está aquí dentro no se trata del número de iniciativas del número de minutos que tenemos para hablar lo esencial es

que mejoren su bienestar y su calidad de vida y para ello sin duda necesitamos dotarnos de unas normas claras y eficaces que nos ayuden en esa tarea

si no somos capaces de ponernos de acuerdo en la mejor solución para las personas que habitamos en este país y en el caso concreto que nos ocupa hoy no puede ocurrir que dediquemos uno hora y veinte porque por cierto no lo vamos a hacer

en ocupar un tema en el que estamos todos de acuerdo máxime cuando en su día ya se debatió esta medida

incumplida no hemos encontrado en un solo informe al respecto entre los archivos del parlamento que supongan lo que dice la disposición adicional segunda de todo lo anterior se deriva que obviamente es necesario incluir en el propio reglamento algún mecanismo de control de nuestra propia actividad parlamentaria

que se toman en esta cámara el resto de obligaciones establecidas de las normas por las que nos debemos regir

recoger alguno de los criterios y contenidos sobre los que ha de versar la necesidad de la reforma garantizando la participación ciudadana la democratización de los nombramientos

posibilitar la conciliación familiar la delegación del voto por fuerza mayor o la consideración del voto telemático la articulación de mecanismos que posibiliten la autofiscalización y por último pero no por ello menos importante la revisión de nuestro reglamento desde una perspectiva de género que posibilite la transformación

de reglamento y gobierno hemos transado con partido popular partido nacionalista y socialistas vascos para que antes de final de año podamos empezar a trabajar en esta línea mila esker

señorías teniendo en cuenta los distintos reglamentos que ha habido para esta cámara la reforma más importante la más sustancial se produjo en dos mil ocho y tanto en mil novecientos ochenta y tres como veinticinco años después el principio que inspiró a ambos proyectos de modificación

lo más importante de la modificación reglamentaria no era tanto su alcance como lograr efectivamente el máximo consenso

la modificación reglamentaria de dos mil ocho permitió al parlamento vasco ser más ágil en su funcionamiento estar mucho más cerca de los intereses y de las preocupaciones de la ciudadanía y avanzar también con mayor transparencia esa modificación del reglamento de dos mil ocho permitió revitalizar

y establecer mecanismos más eficaces de control a la gestión del gobierno y poco a poco se han ido incorporando mejoras como la clarificación de los derechos y deberes de los y las parlamentarias medidas contra el transfuguismo

ante las bajas por maternidad la institución de los plenos de control como mejor mecanismo de rendición de cuentas del gobierno el funcionamiento ágil de las comisiones

reduciendo su número de componentes resolver los empates entre candidatos o candidatas a presidir la cámara crear el estatuto del parlamentario y parlamentaria

o parlamentario por encima de fallos o errores en el sistema de votación

mecanismos para mejorar la participación de la ciudadanía en los trabajos del parlamento y en dos mil once se realizó una modificación puntual

que tuvo una modificación sustancial en dos mil ocho y esa modificación del dos mil once

de ajustes porque se hacía necesario vistas las diversas disfunciones que se habían producido en función de la experiencia que se había mantenido con la aplicación

por eso se avanzó en las comisiones de investigación se propusieron abiertas y se lograron que fueran abiertas se aseguró la presencia de todas las fuerzas políticas en las ponencias se regularon los intergrupos y también la votación de devolución de los proyectos de ley cuando había enmiendas de totalidad también se logró

diversas iniciativas parlamentarias todas estas cuestiones y algunas más han ido incorporándose poco a poco a lo largo del tiempo al reglamento y esto ha permitido que este parlamento gane en credibilidad ante la sociedad y también se facilite el trabajo parlamentario pero también es verdad

cuando por ejemplo a propuesta de los socialistas vascos el parlamento abrió un portal de transparencia que nos ha permitido como institución escalar varias posiciones

y también debemos señalar para poner el tema en sus justos términos que ha bastado que en algunos asuntos fuesen tratados con voluntad política para que se hiciesen efectivos sin tocar el reglamento y en cambio otros temas se han ido incorporando al reglamento con un amplísimo consenso y sin apenas discusión y otros asuntos

porque si necesitamos una reforma profunda habrá que labrar también aquellos acuerdos amplios que se produjeron con anterioridad y también para el futuro

en la pasada legislatura los socialistas vascos presentamos una proposición no de ley para solicitar modificaciones reglamentarias relativas a la mejora de la transparencia la agilización de los trabajos y la participación de esta cámara pedíamos entonces tratar por ejemplo la inclusión reglamentaria de la publicación y fiscalización de la declaración de bienes de todas y todos nosotros la ampliación de la habilitación de los periodos de sesiones

todas ellas cuestiones que no siendo objeto de una reforma sustancial podían abordarse a través del procedimiento previsto en la disposición adicional segunda del vigente reglamento con el fin de conseguir que este parlamento sea una institución más eficaz más ágil más transparente y más participativa

que como no se trata aquí de hacer un reglamento nuevo porque las normas de funcionamiento deben de ser sostenidas en el tiempo y más cuando han contado como decía el señor iturrate

interesante y productivo intentar la incorporación de algunas soluciones

lo más práctico es utilizar el mecanismo de esa disposición adicional segunda del reglamento para hacer revisiones ágiles que nos permitan ir puliendo esta ley

como así lo dice la enmienda que hemos transado y que va a contar

esperamos que el espíritu de amplio y de máximo consenso sea de verdad también ese espíritu el que se imponga en los trabajos que le esperan tanto a la ponencia

entre todos y todas las parlamentarias y parlamentarios de este reglamento un instrumento útil que de verdad facilite la labor parlamentaria y la haga como decía antes más ágil más transparente y más participativa

quisiera agradecer a la señora macazaga que en su primera

magisterio este parlamentario en esta materia citando pero aparte de

corcuera ha mencionado y creo que es importante en este tema era la referencia a la necesidad de que los reglamentos de las cámaras sean fruto del consenso más amplio posible porque

y si alguna virtualidad tienen y debemos defender es que son también derecho y garantía de los derechos de las minorías

por eso decía entonces y usted ha traído a colación que no deben estar al albur

a amplios consensos esa es la voluntad con la que encaramos con la de dar cumplimiento al mandato de la disposición adicional segunda del vigente reglamento

el de voltear del todo el reglamento porque primero consideramos que tenemos un buen reglamento que fue

esos consensos hay un buen trabajo realizado hasta ahora por parte de los servicios jurídicos de la cámara en el que se detectan bien los aspectos

en el reglamento y creo que si queremos además cumplir los plazos que nos hemos dado

que nos ciñamos a ese trabajo porque muchas veces

que denunciaba la señora macazaga no son más que imposibilidad de alcanzar consensos amplios

en este caso también si en el año dos mil diecisiete no somos capaces de alcanzar amplios consensos para la reforma del reglamento pues volveremos a fracasar en ese aspecto pero no en el sustantivo en lo fundamental que es el de tener un buen reglamento y además que responde a la voluntad mayoritaria si es posible a la misma unanimidad
con la que hoy aprobamos la proposición no de ley nada más gracias eskerrik asko iturrate jauna